constructivamente en el trámite de esta ley eso

ha agradecido exclusivamente a sus socios en este caso podemos y

nosotros también hemos trabajado constructivamente en esta ley y además

era necesario actualizar lo relativo a la gestión del patrimonio se daban muchos problemas eso estaba claro hemos hablado todos de ello mi grupo

no presentó enmienda a la totalidad yo creo que eso es un dato relevante en relación con lo que queríamos nosotros

hablar con que queríamos estudiar analizar aportar se podían

mucho margen de mejora una mejora sustancial en lo regulado en este proyecto tanto por lo dicho por los expertos que comparecieron o por esas aportaciones que nos hicieron llegar o por lo que hemos podido estudiar para fijar

la calidad de nuestras enmiendas con la realidad del patrimonio cultural que nos rodea que es mucho y que desde luego hay que gestionarlo y hemos hecho enmiendas

para mejorar cuestiones tan importantes como la accesibilidad en el proyecto de ley

se ha avanzado en lo que es el proyecto de ley para concretar cuestiones pendientes como patrimonio industrial para hacer

aunque tengan que ser mencionadas por una ley especial como el patrimonio documental bibliográfico mejorar cuestiones que tienen que ver con la relación y eso ha sido muy importante también y hemos hecho una aportación nuestra que ha sido asumida la relación que las administraciones

las garantías del administrado ante la administración en gestión de patrimonio cultural también hemos aportado desde luego

hemos trabajado constructivamente en este proyecto de ley pero desde luego desde nuestra consideración y las enmiendas

desde nuestro punto de vista aún le faltan cuestiones por desarrollar cuestiones que hemos planteado que no se han asumido que no se han tenido en cuenta pero nosotros entendemos que no se ha hecho por parte de los grupos

un esfuerzo completo por el acuerdo no se ha hecho un esfuerzo completo por el acuerdo y nosotros hemos estado desde luego en todo caso y en todo punto y lo conocen los

hemos estado dispuestos en todo momento y vuelvo a decir en ese espíritu constructivo pero yo creo que se han desconsiderado buena parte de nuestras enmiendas que son esas que hoy mantenemos desde luego para este pleno se quería una ley de consenso pero no se ha hecho todo lo posible

han conseguido ustedes los grupos que apoyan al gobierno y el gobierno han conseguido un acuerdo completo con eh bildu completo un acuerdo completo con eh bildu y con podemos no yo no voy a hablar de una pinza pero

desde luego los grupos que apoyan al gobierno ahora que se suele hablar de esas cosas que

ha faltado sensibilidad y voluntad con nuestras aportaciones entiendo con algunas de ellas lo tengo que poner de manifiesto porque es el momento el trámite final

estas cosas desde luego lo que no compartimos

que esta ley hace a regulación reglamentaria de un órgano tan importante como es el consejo de patrimonio cultural vasco no nos parece bien es decir en el proyecto de ley

se regulaba por ley el consejo vasco de patrimonio cultural este se regulaba por ley y nosotros desde luego hicimos enmiendas para mejorar la composición del mismo y aspectos que tenían que ver

y a la vista de estas enmiendas decidieron rebajar a regulación reglamentaria es decir un proyecto ley trae un órgano lo regula por ley y sin embargo hay algunas enmiendas que parecen incómodas y pun se rebaja se acuerda con los grupos de la oposición u otros grupos

la organización composición y funciones del mismo es decir ya no será la ley sino que será la voluntad del gobierno vasco la que

pues no lo compartimos no nos parece bien estaba muy bien la idea inicial se podía mejorar pero lo que no está bien es que sea el gobierno vasco en exclusiva quien identifique y quien dirija la composición del consejo vasco de patrimonio cultural después de que el propio gobierno vasco

nos parece mal bien nosotros también hemos presentado otras enmiendas en materia

queríamos que constara una previsión legal en el artículo treinta y uno de que las administraciones competentes

de la expropiación se responsabilizaran del pago del justiprecio y de las gestiones administrativas

bastante importante porque hay mucho patrimonio cultural mueble inmueble en manos de particulares y en ese sentido y en la posibilidad de expropiación serían las administraciones competentes quienes tendrían que garantizar a esos administrados expropiados pues algunas cuestiones entre ellas el justiprecio que es el elemento fundamental de la expropiación se estaba por esa labor es decir también pretendíamos profundizar en garantías para el administrado ante la administración

enmiendas hemos conseguido esa sensibilidad pero en algunas otras no y por eso las mantenemos y

mantenido diferentes enmiendas que fueron aportaciones que no eran unas ocurrencias nuestras sino que fueron aportaciones de expertos que comparecieron en la cámara que consideramos interesantes bueno y que las trasladamos no se asumieron

además cinco han sido las enmiendas que mi grupo ha querido hacer constar que el patrimonio cultural está también ligado

pues era importante destacarlo desde nuestro punto de vista en alguna parte del texto

en la exposición de motivos en los artículos en las disposiciones adicionales

un no rotundo nosotros hemos prestado cinco enmiendas y un no rotundo

de la ley se habla de los bienes culturales muebles e inmuebles inmateriales que ostentan un valor artístico

paleontológico etnológico antropológico lingüístico científico arquitectónico

hasta feminista es decir y sin embargo son incapaces

término religioso o eclesiástico o diocesano o cristiano o católico es

disposición adicional incapaces hemos metido toda la amplia gama de terminología en relación con la descripción del patrimonio

una referencia al mayor número de patrimonio que hay en esta comunidad autónoma es decir es que es increíble es increíble es una falta de sensibilidad señor

en definitiva ustedes han votado esto seguramente por el acuerdo con bildu y podemos que les habrá dicho de ninguna manera patrimonio religioso

en este proyecto de ley o sea que en ese sentido yo creo que ahí no han estado y no entiendo por qué esa negativa cuando es tan obvio la presencia

en nuestra tierra y en nuestra tradición cultural

en lo mueble en lo inmueble y en lo inmaterial o sea que en ese sentido algo ha fallado

de hablar de la colaboración de la cooperación con nuestro entorno que nos rodea pues nos movemos todavía en la obsesión es decir sigue centrándose

iparralde eso sí eso tiene que constar en la exposición de motivos en el articulado

en las disposiciones adicionales y no podemos olvidar quién nos rodea es decir

es que nos rodea castilla león la rioja o cantabria que hasta tenemos enclaves enclaves con patrimonio cultural

es decir y no puede haber una mención a que podemos colaborar con otras administraciones de nuestro entorno es decir en la gestión del patrimonio cultural qué patrimonio cultural linda con castilla y león con burgos con cantabria con la rioja eso sí navarra e iparralde es decir

lo completa que debiera ser y también queríamos no me da tiempo

otra serie de enmiendas como incrementar el dinero público

de la inversión pública destinada a la protección del patrimonio cultural

hemos presentado setenta enmiendas treinta y cinco han sido marcadas por la transacción han sido aceptadas y otras treinta y cinco han sido rechazadas y son
señora presidenta la que este grupo mantiene en este pleno muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

barrio ha aceptado ha incorporado gran parte de las enmiendas de los grupos de elkarrekin podemos

pero también gran parte de las que presentó el partido popular es cierto

pero no puede menoscabarse la importancia que ha tenido el trabajo del señor barrio en la

hasta el último momento y así quería decirlo porque ha sido importante su participación y porque también su participación aun no habiéndose aceptado todas las enmiendas ha hecho mejor

que entró en este parlamento todas estas contribuciones en el trámite de ponencia lo he dicho han reforzado las potenciales de esta nueva ley de patrimonio del país vasco es una ley que se sitúa a la vanguardia de las necesidades de la nueva sociedad

puesto que recogía categorías de patrimonio que no se habían contemplado en el ordenamiento jurídico de la época

que respondiese a esa demanda de incorporar al ordenamiento jurídico la evolución conceptual que el patrimonio cultural ha experimentado en los últimos años en el que se ha ampliado notablemente la concepción del mismo los elementos también que de él forman parte respondiendo a esta necesidad entró un proyecto que se insisto ha mejorado con las contribuciones pactadas entre los grupos parlamentarios y en la aprobación de esa nueva ley estamos onartu

a resultas como he dicho de las nuevas tecnologías o la historia jamás contada del papel de las mujeres

de su historia por fin sí están en una ley comenzamos a atrevernos como dice la exposición de motivos

recogiendo un enfoque integrador del concepto de patrimonio que permita reconstruir los sentidos y los significados del imaginario femenino como gran valor siempre pero también como valor cultural

en este caso en el patrimonio cultural fue una enmienda de elkarrekin podemos que hemos consensuado entre

por una visión del patrimonio que refleje la pluralidad de identidades de la sociedad a la que pertenecemos el patrimonio cultural de un país y su protección

es decir la protección de nuestro patrimonio señorías no se puede patrimonializar

de una determinada comunidad política ajustada a una ideología o sentimiento de pertenencia si se hace así como elemento de construcción

contra otras sería un patrimonio y una protección de nuestro patrimonio que es de todas y de todos muy poco pudoroso

de una sociedad la vasca en la que se integran una diversidad de identidades abiertas plurales y vívidas y en definitiva libres con lo que nos ha costado ser libres

límites en una determinada colaboración con iparralde

límites administrativos a una unión cultural evidente con esas dos comunidades y que no podemos negar porque

de todo nuestro devenir histórico como país pero tampoco es verdad que se niegue la colaboración con otros territorios que también

y a esa gestión presente de nuestro patrimonio

debemos mirar a lo lejos mirar a lo alto y no conformarnos reflejar esa rica variedad de identidades compartidas que es lo que trata y creo que ha conseguido reflejar esta nueva ley incluyendo sensibilidades y perspectivas siquiera imaginadas anteriormente

femenino esta nueva ley es valiente o audaz

en lo que se refiere a tratar de resolver la difícil gobernanza institucional vasca la actual lth presenta numerosas lagunas en la gestión cultural vasca careciendo una visión cohesionada y coordinada de toda la arquitectura institucional la nueva ley de patrimonio

aunque sea de una manera sectorial y limitada el patrimonio

contemplando los oportunos cauces de coordinación y colaboración interinstitucional que nos permitan a todas las vascas tener un país que gestione sus recursos públicos

en ese sentido yo creo que también es la medida de incorporar el órgano interinstitucional de patrimonio cultural vasco que buscará la coordinación entre las instituciones vascas competentes y también

que esta nueva ley hace mucha incidencia en ganar en participación y en democratizar

logrado y que quería señalar porque la cultura y su protección no es responsabilidad únicamente de las instituciones tampoco solo de los especialistas sino que toda la ciudadanía vasca tiene un papel fundamental como protectora y portadora de ese bagaje cultural que nos conforma como sociedad

porque lo han dicho de una manera u otra todos y todas las ponentes y el propio consejero es una

nuestra historia como país a través de transferencia de habilidades de experiencia de tecnología y de proceso

y aun en nuestro presente podemos decir que esta vez a más con este título específico dedicado

expuesto en especial consideración finalizo agradeciendo a las personas

al grupo de personas que en mi partido y en mi grupo me han ayudado

y especialmente al resto de ponentes señor estarrona

y señora garcía también a la letrada que nos ha ayudado la señora nicolás os puedo decir que he aprendido de patrimonio cultural muchísimo

era un buen proyecto de ley era innovador partía con un importante acuerdo interinstitucional que tranquilizó mucho la gestión en la ponencia

hoy de verdad que pienso que pese a las dudas de carmelo hay una ley mucho mejor

enriquecida por las aportaciones de los distintos grupos políticos de la cámara ni pinzas ni pincitas izquierda o derecha nacionalistas

que han demostrado todos todas de verdad responsabilidad y generosidad en el trabajo de una manera el patrimonio cultural que une

y sentimientos de pertenencia y que demuestra que si queremos

entre todas cuando se trata de avanzar en el interés y bien común de la ciudadanía vasca así lo hemos hecho con uno de los elementos que nos identifican como país

quiero subrayarlo más allá incluso de nuestras diferencias políticas muchas gracias eskerrik asko romero

egun on denoi eskerrik asko mahaiburu andrea desde elkarrekin podemos queremos poner en valor la importancia de contar con una nueva ley

tanto de las profesionales del sector como de los diversos agentes sociales y una necesidad para asegurar una adecuada protección del patrimonio vasco

de forma adecuada la anterior ley que regulaba el patrimonio cultural vasco data del año mil novecientos noventa y esta nueva ley busca no solo

ha experimentado en los últimos años así como mejorar la gestión integral su investigación conservación y difusión sino también a responder a los retos futuros

de trámite parlamentario y de trabajo en la ponencia hoy será ratificado por la cámara vasca con un amplio consenso

por la defensa y extensión de los derechos sociales hemos reivindicado siempre el derecho a la cultura como un derecho subjetivo entendido como el conjunto de prácticas expresiones lenguajes e ideas que nos vincula a una manera de entender la sociedad y el mundo en que vivimos un conjunto de rasgos distintivos

que nos permiten reconocernos y compartir con los demás un modo de vivir y de pensar como afirma la unesco en su declaración de mil novecientos ochenta y dos

a través de la cultura las personas se expresan toman conciencia

se ponen en cuestión buscan nuevas significaciones y crean obras que las trascienden

de las cuestiones que dentro de la comisión de cultura euskera y deporte más nos preocupaban y hemos trabajado desde que entramos en esta cámara y por eso hoy queremos expresar nuestra satisfacción

la protección del patrimonio cultural vasco para nuestro grupo parlamentario esta nueva legislación aborda las nuevas concepciones y retos a los que se enfrenta en las últimas décadas el ámbito del patrimonio una de las más importantes es el patrimonio inmaterial el patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos sino que comprende también

y transmitidas a nuestros descendientes como tradiciones orales artes y espectáculos clubs sociales rituales actos festivos conocimientos y prácticas relativas

saberes y técnicas vinculadas a la artesanía tradicional y que nos ayudan a entender mejor nuestra identidad y nuestra propia historia

es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural

de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida la importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación cultural en sí sino en el acervo de conocimientos y técnicas

el valor social y económico de esta transmisión de conocimiento es pertinente para los grupos sociales tanto minoritarios como mayoritarios de una comunidad

a un mismo tiempo integrador representativo y basado en la comunidad por tanto el parlamento vasco aprobará hoy

enriquezca y mejore el texto presentado por el gobierno nuestras enmiendas han introducido mejoras entre las que queremos destacar la puesta en valor del patrimonio industrial el patrimonio feminista

así como la accesibilidad universal y la transparencia la nueva legislación modulará mejor el equilibrio entre los valores culturales a preservar y adecuará su puesta en valor para su viabilidad futura además establecerá claramente los criterios que deben guiar las actuaciones relacionadas con la conservación recuperación y puesta en valor de los bienes culturales

órganos de gobernanza más eficaces plurales y transparentes a la hora de abordar la coordinación interinstitucional y la participación de los agentes sociales

se ha conseguido un texto más completo que el presentado inicialmente por el gobierno y queremos detenernos en tres cuestiones fundamentales presentadas por elkarrekin podemos en primer lugar en relación al patrimonio industrial se ha creado un título exclusivamente para abordarlo

una identidad vasca que durante siglos se ha caracterizado por compatibilizar formas de vida y producción respetuosas con el paisaje y la conservación de la biodiversidad

se ha conformado estableciendo un vínculo característico y especial con las formas de trabajo los lugares los oficios y los edificios que constituyeron elementos singulares de la revolución industrial de euskadi una revolución que trajo consigo

de innumerables ciudades y pueblos de la geografía vasca dotándoles de un significado distinto y característico la fábrica como lugar de trabajo

no solo la fuente de los ingresos de las familias sino el espacio de reivindicación de la dignidad de la socialización y asociación y de la construcción de un futuro mejor para las siguientes generaciones por ello nos parecía importante introducir en el texto la protección del patrimonio natural y paisajístico e industrial como elemento identitario de muchos de nuestros pueblos

de sectores como el agroganadero y el pesquero intensivos y el inmobiliario evitando que puedan ser objeto de actuaciones que impidan

o desvirtúen su carácter además desde elkarrekin podemos

del patrimonio feminista que recoge un concepto de patrimonio

como valor cultural y que sirva para facilitar la acción de políticas públicas

como elementos diferenciales el legado y el aporte femenino hemos querido realizar una reflexión sobre la propia conceptualización de lo que es el patrimonio y garantizar que no solo abarque los bienes producidos y ostentados

sino también en otros recursos herencias y saberes de grupos sociales históricamente invisibilizados como ha sido el caso

en definitiva un concepto de patrimonio con un enfoque integrador de lo público de lo privado y de lo productivo y lo reproductivo que permita reconstruir los sentidos y significados del imaginario femenino como valor cultural con elementos

por último y como tercera gran aportación que elkarrekin podemos ha logrado introducir es la de que se incluya en el objeto de la ley en el artículo uno la ley de accesibilidad universal para que todas las ciudadanas puedan disfrutar del patrimonio vasco hay que entender la ley de patrimonio cultural vasco concebida con el objeto de garantizar no solo su protección y su conservación sino también para garantizar su conocimiento su investigación y puesta en valor

para garantizar las condiciones de accesibilidad universal y el derecho de acceso al patrimonio cultural

con independencia de su estrato social su raza o género y así mismo prestar especial atención a las personas con discapacidad por lo tanto debe respetar los artículos nueve y treinta de la convención de naciones unidas sobre derechos de las personas con discapacidad el real decreto legislativo

y de su inclusión social y la ley de la promoción de la accesibilidad

espacios públicos edificaciones y sistemas de información y comunicación normas ya que están vigentes en nuestra comunidad desde elkarrekin podemos queremos hacer hincapié

conservar y proteger el patrimonio de euskadi si no lo podemos disfrutar todas las ciudadanas y hemos trabajado por garantizar una ley

con la accesibilidad universal y con la igualdad de oportunidades para que en nuestra comunidad el patrimonio sea accesible e inclusivo por todo esto votaremos a favor de esta norma la cual gracias

de grupos responderá de manera más eficaz a los actuales retos que conlleva la salvaguarda defensa y preservación del patrimonio cultural vasco mila esker

josu carmelo edurne eta rafi

los gobiernos no digo este todos los gobiernos del mundo y todos los políticos en general utilizamos es que realmente democratiza y lo hace en primer lugar

un dilema verdad y es cómo se protege un bien inmaterial

pero cómo se protege el bertsolarismo por ejemplo pues una de las enmiendas que hemos incluido

con el gobierno lo que hizo fue categorizar

los bienes inmateriales de forma que detrás de cada categoría voy a poner el ejemplo

existiera una mesa de trabajo entre el colectivo portador es decir las personas que disfrutan y aman el bertsolarismo en este caso podrían

y el gobierno es decir que no fuera algo declarativo es decir el gobierno considera fundamental el bertsolarismo en el patrimonio inmaterial vasco no más allá de eso

el hecho de que la cultura inmaterial se viva y se trabaje desde abajo porque en el fondo

los viven los colectivos portadores las personas que las disfrutan que las conocen y que las aman por tanto

creo que también ha sido ha tenido un cierto atrevimiento a la hora de plantearlo

y es que todos los bienes catalogados en planteamientos urbanísticos municipales todos los bienes que catalogan los municipios y las ciudades son

a la protección que recoge la ley que vamos a aprobar hoy si estamos hablando de que el patrimonio cultural es aquello que se conoce y que después de conocerlo se ama se estima porque si no

significa que lo conocemos y quién conoce mejor y de forma más cercana

en este caso material o también inmaterial que un ayuntamiento y por tanto a raíz de la aprobación de esta ley posiblemente los bienes declarados

y que van a ostentar de aquí en adelante un régimen de protección básico van a subir exponencialmente pero creo que va a ser bueno para la protección del patrimonio vasco en tercer lugar limitamos mucho el silencio administrativo que es un derecho que tienen todas las administraciones

cuando damos mayores cauces de participación cuando casi alentamos cuando casi alentamos a ciudadanos y a asociaciones

creo que es importante que después la administración conteste y diga sí o no y además se va a hacer en un plazo mucho más breve actualmente por tanto tercera vía por la cual la participación de la ciudadanía digamos se

en cuarto lugar está el consejo asesor del patrimonio anteriormente y como ocurre en gran parte del mundo existe un cierto monopolio a la hora de decir

normalmente lo tienen las instituciones en este caso lo tenía el gobierno vasco el hecho de que haya un consejo formado por ejemplo

asesores independientes expertos independientes de la universidad de ámbitos que guardan este conocimiento y hagan y formen parte de ese proceso deliberativo es también democratizar el patrimonio

y por último se ha insistido en que la información acerca de los procesos en las audiencias públicas no solamente se dirija a los afectados sino que también se haga a las personas interesadas pueden ser asociaciones o personas físicas que tengan entre sus preocupaciones

típica del pueblo por tanto son varias las vías en las cuales la participación ciudadana y la democratización

en euskadi de una forma pionera porque todos teníamos una impresión y un peso

ha hecho usted hincapié en el tema del patrimonio religioso que ya viene

que no existe no existe y no voy a establecer

no existe en ninguna ley autonómica apoyada por mayorías absolutas del partido popular ni en madrid ni en galicia protección más efectiva a ningún patrimonio entre dos también el religioso por tanto bueno

utilizado mis compañeros de viaje y también el señor

sí señora presidenta con su permiso desde el escaño brevísimamente porque no ha habido réplica lógicamente a lo que

sí que quiero decir que efectivamente era necesario trabajar una ley de estas características pero quiero decir que podía haber sido mejor es decir

en otras leyes no hay determinadas regulaciones pero

se identifica o se regula el patrimonio industrial

o sea que en ese sentido nosotros lo que queríamos ya que se hacía en el ámbito de la aplicación de la ley del artículo dos

tan amplia y el ámbito de aplicación tan amplio una definición y un detalle tan concreto de las formas de las expresiones del patrimonio además en sus ámbitos mueble inmueble e inmaterial pensábamos que podía haber

y justo sobre todo la oportunidad de haber hecho esa referencia que tiene que ver con lo artístico con lo histórico

pero tiene muchas acepciones no lo queríamos definir como cristiano o católico

incluíamos en esa expresión yo creo que eso ha sido un déficit de este

hemos hablado antes de los otros de algunas de las cuestiones que queríamos en relación con la expropiación y el justiprecio con relación con la inversión en bienes culturales o en relación con alguna de otras cuestiones que han quedado ahí pero bueno decir que bueno eso lo vamos a votar ahora se va a rechazar pero sí que quiero poner de manifiesto

se ha hablado de la democratización de la ley que efectivamente se ha avanzado seguramente en esos aspectos se ha regulado el patrimonio inmaterial de una manera que

va a ser complicado de gestionar pero interesante también de ver cómo se gestiona porque es necesario hacerlo

lo que ponía de manifiesto de que una ley que prevé la creación de un órgano tan importante como el consejo

regulado en una ley regulado su composición su organización y sus funciones en el trámite legislativo se decida rebajar

la regulación legislativa a regulación administrativa yo creo que eso es un profundo error

que la ley hubiese fijado mucho mejor que un reglamento lo podíamos haber debatido lo podemos haber estudiado nosotros teníamos propuestas de ampliación

o con las funciones o con la organización del consejo vasco de patrimonio hemos echado en las anteriores leyes algunos déficits en relación con órganos que no han funcionado nosotros queríamos que hubiese un órgano que sí funcionase al servicio

al servicio del patrimonio yo creo que el hecho de haber rebajado en un proyecto de ley una cuestión que venía fijada por regulación legal a regulación administrativa es un profundo error y en relación con lo que yo comentaba antes también de nuestro entorno

como la eurorregión aquitania euskadi y navarra es decir es que hay más

parte de su rico acervo cultural muchas muchas comunidades y esas de alguna manera aunque sea genérica se podían haber dicho aquitania navarra y otras comunidades de nuestro entorno qué fácil hubiese sido

este proyecto de ley muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

desde el escaño no era mi intención no contestarle yo creo que en la intervención le he dado respuesta a por qué

con esta nueva ley lo creemos sinceramente no entendemos que haya esa desviación reglamentaria en esos términos expuesta y que eso vaya a perjudicar creemos que la voluntad de verdad ha sido dar un salto cualitativo también he respondido con respecto a las relaciones de la cultura en la comunidad autónoma vasca con iparralde con navarra

lugares lo he dicho es innegable como comunidad que nosotros no pongamos de manifiesto esa relación que no tiene

y que no acaba ahí por supuesto porque también nos unen con el resto

en la propia ley lazos culturales ahí tenemos el camino de santiago que ha sido

no es cierto no era la intención yo sé que usted lo conoce que sigue en el debate de su posición pero lo único que se me ha olvidado

patrimonio religioso como la religión está tan presente en nuestro país

y la referencia al patrimonio religioso mucho menos los presupuestos de cultura en cualquier institución de la comunidad autónoma del país vasco que siempre han estado vinculados

religioso no era esa la intención y por lo tanto era la manera

por lo tanto me quedo con lo positivo señor barrio usted también ha trabajado de los acuerdos

de la referencia al patrimonio feminista y esa ha sido la voluntad de todas lo ha dicho el señor

podrá ser mejorable pero creemos que el esfuerzo ha valido la pena gracias eskerrik asko romero

buenos días también a los representantes de las asociaciones de comerciantes por su presencia para esta iniciativa que presentamos

el grupo popular y el resto de grupos de la oposición isiltasuna mesedez

iniciativa que hace referencia a la necesidad de modificar nuestra normativa referente a la actividad comercial y concretamente a la implantación

establecimientos comerciales el plan sectorial de actividades económicas y equipamientos comerciales de dos mil cuatro aprobó en esta cámara con un amplio consenso la limitación de superficie máxima para equipamientos comerciales la directiva dos mil seis del parlamento europeo y su trasposición a nuestra normativa modificó el régimen jurídico

en su disposición final establecía el mandato para la revisión

para realizar esta adaptación esto que no se modificó en su momento derivó en un recurso en dos mil diez ante el acuerdo del ayuntamiento de san sebastián de aprobación definitiva del plan general de ordenación urbana de donosti

supremo que en septiembre de dos mil quince mediante sentencia del tres de septiembre declaró nulos las limitaciones de emplazamiento y tamaño de equipamientos comerciales establecidos en el pts de actividades económicas y equipamientos comerciales

proscritas tanto por la directiva europea y por la ley diecisiete barra dos mil nueve y que solo se utilizarán limitaciones por razones justificadas

imperiosas de interés general entre las que se encuentran las relativas a la protección del medio ambiente la ordenación del territorio incluida la planificación

sentencia que nos dice que lo que procede ahora es otorgar rango legal a los criterios de ordenación que queremos aplicar para seguir con el objetivo de propiciar un modelo de equilibrio comercial siendo la actividad comercial un factor determinante en nuestros pueblos y ciudades el comercio

un elemento básico de nuestro modelo de vida social además impulsa la economía local favorece las relaciones sociales y potencia la actividad de los cascos urbanos en la interpelación que en diciembre presentábamos al señor consejero sobre este asunto nos indicó que estaba en la idea de comenzar la elaboración de una iniciativa legislativa que

conociendo los plazos que un anteproyecto de estas características lleva aparejados para su tramitación y con una legislatura avanzada dudosa que su aprobación pudiera darse en esta legislatura por otra parte

ha venido provocando una avalancha de autorizaciones municipales para la implantación de centros comerciales en la periferia de cascos urbanos o en polígonos industriales especialmente en gipuzkoa que requiere de una regulación en cuanto a su implantación

el caos que la ausencia de normativa está provocando ante estos hechos los grupos de la oposición entendimos que lo que procedía en este momento era la presentación a trámite de la proposición de ley que hoy presentamos de modificación de la ley siete barra mil novecientos noventa y cuatro de veintisiete de mayo de la actividad comercial en materia de implantación y ampliación de grandes establecimientos comerciales

que la hicimos nuestra y la presentamos con el objetivo de avanzar en el propósito

estos cuatro meses y a propuesta del gobierno hemos trabajado en acercar posiciones en un texto que puede acercarse al objetivo que perseguimos impulsar un modelo de urbanismo comercial y de ocupación y utilización racional del territorio con los usos comerciales que permitan un desarrollo sostenible de nuestros barrios de nuestros pueblos y ciudades basado en los principios de cohesión social

necesidades y expectativas del conjunto de los vecinos de los ciudadanos tengan o no

también una cohesión urbanística un modelo de ciudad donde se armoniza el uso residencial con las actividades comerciales de servicios de deporte y de ocio y una cohesión medioambiental evitar desplazamientos innecesarios que provoquen congestión

e incrementen la contaminación está claro que los formatos de establecimientos comerciales periféricos están en un proceso de madurez y de estancamiento que además el comportamiento del consumidor vasco en función de la edad pone de manifiesto que a mayor edad

y menor evasión a formatos comerciales externos

la población de dieciocho y treinta y cuatro años el gasto lo reparten al cincuenta cincuenta entre

de sesenta y cinco años lo hacen en un ochenta veinte ochenta por ciento consumo

si a esto añadimos los datos del eustat que dice que en doce años en el dos mil treinta y uno la población mayor de cincuenta y cinco años será

que la mayor de setenta años será el veintiuno por ciento de la sociedad vasca que esto va a modificar nuestras ciudades y nuestra forma de vida claramente los centros comerciales periféricos no tienen ningún futuro por eso desde el grupo popular estamos satisfechos de que hoy se pueda tomar en consideración

de poder iniciar un trámite en esta cámara para avanzar ordenación necesaria de manera imperiosa para acabar con el caos que se está produciendo en algunas autorizaciones y para que podamos aprobar

de regulación territorial de grandes establecimientos comerciales ese es el interés que desde el grupo popular nos ha motivado a presentar esta iniciativa junto con el resto de los grupos de la oposición grupo eh bildu

elkarrekin podemos esperemos que el gobierno también propicie que este trámite sea favorable y que podamos avanzar hacia un texto en el que todos podamos coincidir y que nos propicie eso que pretendemos como les decía que se regule la

que hoy la tenemos en vacío muchas gracias eskerrik asko

se ha introducido con fuerza en la actual política de la unión europea donde la buena dirección a tomar pasa por la urgente transición hacia un cambio de paradigma

se protege el capital natural y se maximizan los recursos materiales y energéticos para que estos permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo de producción y consumo

se reincorporan al sistema la unión europea está decidida a promover seriamente la transición hacia un modelo de economía circular

del uso de recursos fabricación de productos consumo y eliminación de deshechos para nuestro grupo parlamentario hay que traer al debate de hoy

una transición que abarca a todos los órdenes de la sociedad desde la forma en que producimos hasta la forma en que consumimos y en lo que ahora nos ocupa también con respecto

en la forma en que diseñamos la actividad comercial con esta situación es un hecho

se convierte en inviable en determinadas zonas de gipuzkoa la apertura de nuevos centros comerciales supone dar la puntilla al comercio de barrio además de retroalimentar un modelo de consumo insostenible este tipo de políticas

de la estrategia de soberanía alimentaria y comercio de proximidad que desde elkarrekin podemos hemos defendido siempre para nosotras es imprescindible

medioambiental y económico por lo que hay que tomar medidas para garantizar la protección y mejora de los entornos comerciales urbanos especialmente en los centros históricos y los impactos negativos

en definitiva los actuales modelos productivistas y consumistas deben encarar de forma prioritaria una transición

a la economía de ciclos cerrados para que el sistema económico sea más eficiente racional y sostenible

y de manera indiscriminada va en contra del interés general de la sociedad no solo porque no favorece al comercio de proximidad y fomenta

atenta directamente contra el medio ambiente y la sostenibilidad de los municipios donde se construyen o amplían hay que tener en cuenta que es necesario

suelos para proteger los espacios naturales y el medio rural evitando la construcción de nuevas carreteras así como el incremento de los desplazamientos forzados en automóvil y la desertización de las zonas urbanas en varias sentencias del tribunal de justicia de la unión europea se describe el concepto razones imperiosas de interés general al que se hace referencia en determinadas prescripciones y que abarca la protección del medio ambiente y del entorno urbano incluyendo la planificación y rural además como consecuencia de la inexistencia de limitaciones normativas

las ciudades pierden vida y mucho más la periferia los barrios y los pueblos por tanto y siguiendo con el camino ya emprendido por otras normas como la ley del suelo también es necesario que en la ley que regula las actividades comerciales se ponga el punto de mira

a esta transición cabe recordar que la iniciativa que hoy presentamos es la concreción de un acuerdo al que se llegó en esta cámara hace casi un año

se aprobó en este parlamento una proposición no de ley en la que se instaba a acordar la necesidad de regular la distribución de la oferta comercial tomando como referencia cinco criterios una ordenación del territorio adecuada la necesidad de una planificación de transportes

la protección del medio ambiente la necesidad de garantizar la accesibilidad de toda la población

a terminar la tramitación del nuevo plan territorial sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y ordenación de grandes establecimientos comerciales y que recogiese la prohibición de implantar nuevos grandes establecimientos comerciales o

existentes a la modificación del artículo trece de la ley de actividad comercial y no adoptar medidas que facilitasen la apertura o ampliación

espacios comerciales recordaba en su intervención en aquel pleno mi compañera

que ya habían pasado más de dos años desde que en marzo de dos mil dieciséis

de iniciar la tramitación de la revisión del plan territorial sectorial de actividades económicas y equipamientos comerciales

del tres de septiembre de dos mil quince fallo que declaraba nulas de pleno derecho las determinaciones que imponían limitaciones a la superficie máxima para equipamientos comerciales

casi un año después seguimos igual habitualmente en esta cámara se dice reconocer y valorar el pequeño comercio pero la pasividad

la supuesta prisa en las recalificaciones contrasta con estas declaraciones de los partidos que sustentan al gobierno insisto llevamos más de tres años sin ningún límite legal para restringir la apertura y ampliación

con lo que ello supone de inseguridad jurídica ante la inacción

desde elkarrekin podemos siempre hemos estado de acuerdo con las asociaciones de comerciantes y con la propuesta que hoy presentamos que parte

lópez de ocariz de una de las asociaciones porque entendíamos

y que pasaba por supuesto por la modificación del artículo trece de la ley de actividad comercial y por ello estamos aquí debatiendo una proposición de ley

y que se ahonde en los criterios en materia de implantación y ampliación

con el objetivo de otorgar rango legal a los criterios de ordenación

en aras de la defensa del interés general una iniciativa que hay que recordar que registramos en diciembre de dos mil dieciocho y que en estos meses hemos ido trabajando

para lograr el máximo consenso posible porque entendemos que es una ley que no solo nos piden desde el sector porque parte de ellas mismas sino que sin el consenso y el apoyo de la mayor parte de las fuerzas perdería todo el sentido y toda la importancia que nosotras entendemos que tiene

no solo entra a regular aspectos relativos a las determinaciones de ordenación territorial que entendemos

sino que aborda aspectos que no encajarían en una norma relativa a la ordenación territorial y que creemos

dedicada a la actividad comercial la regulación en el ámbito de la ordenación de los equipamientos comerciales y en concreto

a preservar la consecución de determinados fines ha sido objeto de extensos análisis jurisprudenciales tanto por parte del tribunal de justicia de la unión europea como

y la distribución comercial lo es puede ser excepcionalmente condicionada a un régimen de autorización siempre que este no sea de carácter discriminatorio

una medida menos restrictiva por ir terminando la modificación cumple con todos los condicionantes que establece europea se justifica en motivos de interés general en la preservación del medio ambiente en la revitalización de los centros de los pueblos y ciudades

con los criterios de proporcionalidad y discriminación y todas las modificaciones están avaladas por la práctica y la jurisprudencia de la unión europea por no seguir

junto con el partido popular y eh bildu quiero terminar evidenciando que se trata de

defendamos el medio ambiente y la revitalización del comercio urbano además de fomentar el impulso del comercio de proximidad

un modelo de consumo y de producción más justo y equilibrado que se proyecta evidentemente en la necesidad de la limitación de la implantación y ampliación

en euskadi que es exactamente lo que hoy venimos a debatir milla esker

mi compañera me ha oído hablar del pts me preguntaba ayer tienes punto mañana sí qué tema

los compañeros de prensa escapan cuando les voy con el pts el resto de compañeros del grupo piensan que el pts es algo así como el anticiclón de las azores algo que siempre ha estado ahí que siempre va a estar ahí pero no

a la fase resolutiva no quiero ponerme grandilocuente pero voy a traer a colación una cita de churchill cuando termino la batalla de inglaterra y dijo bueno esto no es el final

y yo creo que con este tema que se ha prolongado tanto que se ha prolongado demasiado por fin hoy vamos a llegar

causa en la sentencia del supremo queda abierta la puerta para la proliferación indiscriminada de grandes superficies y de la ampliación de las ya existentes

unos meses después de la sentencia solicitamos la comparecencia de la anterior consejera de ordenación territorial que hoy es compañera nuestra en esta cámara que no está en este momento

para recomponer la situación teniendo en cuenta que el propio tribunal supremo había aceptado que existen determinadas causas en virtud de las cuales de forma legal

se puede restringir la implantación de centros comerciales no se nos dio ninguna concreción no se nos dijo nada más

determinados preceptos del plan territorial de centros comerciales pero no se habló ni de contenidos ni de plazos para recomponer la situación anterior ante ello en marzo del dos mil dieciséis trajimos a esta cámara una proposición no de ley en la que precisamente se pedía eso una hoja de ruta y unos compromisos en torno a contenidos

no tuvimos la posibilidad de sacar adelante esa propuesta terminó la legislatura y empezó esta y seguimos presionando al gobierno y preguntando en este caso al señor arriola qué intención tenía a principios de legislatura nos dijo que sí

han pasado o pasaron prácticamente dos años de dimes y diretes de propuestas ambiguas de propuestas variadas en torno a esa nueva

tiempo estancado en el cual han proliferado los intentos de

superficies especialmente en gipuzkoa y dada esa situación en dos mil dieciocho como también se ha mencionado una nueva proposición no de ley que es en este caso sí recibió el respaldo mayoritario de la cámara

y hacer una ley o modificar la ley para darle soporte porque no nos fiamos ya a esas alturas de que el gobierno tuviera una voluntad real y cuando en octubre del año anterior

el gobierno dice que va hacer una ley y que por tanto aparca los trabajos de más de o de casi dos años

que hay que tomar la iniciativa y que hay que proponer la modificación de la ley por parte de la oposición como se ha dicho también en este caso a petición de una asociación del comercio

eskaintza biderkatzea eta salmenten jaitsiera eta esaten den moduan qué puede salir mal si doblamos la oferta comercial en un sector que está en franco retroceso pues qué puede salir mal pues todo puede salir mal

llevado adelante los propios grandes centros comerciales hubieran tenido problemas porque no hay una demanda para absorber

pero por el camino hubieran barrido a los pequeños como dice el proverbio africano

es la hierba la que sufre y si realmente esto era un despropósito desde el punto de vista incluso

en el ínterin y mientras se hubieran producido algunas de estas aperturas el pequeño hubiera sufrido y en algunos casos hubiera desaparecido en estado unidos se habla

para definir la cadena de cierres de grandes establecimientos por el cambio de pautas de consumo pero hubiéramos asistido por lo menos

ateratzen badugu amaiera emango zaio egoera onartezin honi no es posible que sigamos en esta situación era necesario acotar era necesario

anterior porque es un equilibrio que buscamos tanto de cara a la ordenación del territorio como al equilibrio interno entre los diferentes formatos comerciales

que la aspirina además de quitar el dolor de cabeza es buena para el corazón por su efecto anticoagulante y previene los infartos por lo menos antes se decía eso no sé si habréis cambiado de opinión los médicos como con los huevos y otras cosas que

y todo el mundo convendrá en que un infarto es peor que un dolor de cabeza

nosotros aquí vamos a poner hoy limitación a los centros comerciales desde un punto de vista de la organización del territorio tenemos razones para ello

consecuentes y toleradas por la legislación europea pero además como efecto secundario positivo vamos a restablecer un equilibrio entre los diferentes formatos comerciales

no se puede permitir que haya ventajas añadidas en términos fiscales o en términos como en este caso de posibilidades

para unos sectores en detrimento de otros esta ley ya voy concluyendo podía estar prácticamente ya en vigor

seguido la tramitación lógica y los tiempos ordinarios de la tramitación el gobierno nos pidió tiempo para negociar y para intentar llegar a un acuerdo y ese tiempo se lo concedimos pero ya ha llegado un momento en el que hemos decidido dar pie a esta tramitación porque nos hemos dado cuenta que en determinados aspectos no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo porque tenemos discrepancias de fondo cuando empiece el plazo de tramitación seguiremos escuchando no se trata de imponer

se trata de llegar a la mejor ley posible no se trata de meter el dedo en el ojo al gobierno a pesar de que por muchas de las cosas que he mencionado

sino se trata fundamentalmente de recuperar el equilibrio territorial y comercial

para mejorar la vida de la gente y todos y todas los que estemos en esa tarea nos encontraremos

el grupo socialista intervenir en este turno sino en el de explicación de voto pero creo que algunas de las intervenciones que hemos oído aquí no dejan más opción que la de por lo menos intentar aclarar

del gobierno vasco y también la del grupo socialista respecto a esta proposición de ley nada que decir nada que objetar a la intervención que ha realizado

compartimos absolutamente toda su argumentación excepto la cuestión de la presentación

proposición de ley y le explicaré porqué lo demás absolutamente nada objetable miren los socialistas vascos no apoyamos

con nuestro voto a favor de esta proposición de ley porque entendemos que este documento que hoy nos traen aquí a la toma en consideración no tiene las suficientes garantías jurídicas

en el ámbito del comercio no tiene las suficientes garantías jurídicas para que una vez planteados los recursos por los operadores comerciales en los tribunales los ayuntamientos que serán los que en última instancia concedan o no autorizaciones a la implantación o a la ampliación de las grandes superficies comerciales puedan tener garantías jurídicas para que

que acabar pagando esas reclamaciones grandes reclamaciones pecuniarias que realizan esos operadores comerciales

porque entendemos que reitera criterios que ya han sido anulados tanto en el plan territorial sectorial de creación de suelo público para actividades económicas y

son criterios ya anulados por sentencia en el dos mil quince

de ese plan territorial sectorial y además también este documento reitera criterios que también contravienen el derecho comunitario y el derecho estatal

de las máximas garantías jurídicas para que puedan los operadores como digo los ayuntamientos las instituciones locales que van a ser las que en última instancia van a tener que ser al menos consecuentes con las decisiones que adopten y seguramente todos estos temas en tribunales lo sabemos porque ha venido así ocurriendo en otras comunidades autónomas y también lógicamente acabará siendo así en la comunidad autónoma vasca

de esta proposición de ley ni el fondo ni la regulación material que en ella se plantea como digo porque vuelve a reincidir en criterios que ya han sido anulados

entenderíamos una proposición de ley que acogiera una de las tres alternativas del plan territorial sectorial que el gobierno vasco ha estado trabajando y que puso llegó

de esa modificación del plan territorial sectorial hubiesemos entendido que se acogiera esta proposición de ley a lo que es la segunda alternativa la de restricción a las

pero bajo criterios de ordenación territorial pero esto no es así la regulación material de esta proposición de ley que nos traen aquí a la toma en consideración va más allá

las grandes superficies en cuestión de metraje de esas superficies que las iguala en lo que es igual o superior a setecientos metros cuadrados cosa que antes no estaba entendemos y compartimos que el espíritu del pts del plan territorial sectorial del dos mil cuatro que logró

pudiera ser objeto también de esta proposición de ley pero no vuelven ustedes a reincidir en hablar del comercio minoritario de la defensa del comercio minorista

estemos en contra del pequeño comercio lo que significa es que para hacer una regulación material que proteja

o que limite y restrinja la implantación o la ampliación de las grandes superficies comerciales debemos de hacerlos

del pequeño comercio debemos restringir debemos limitar con razones jurídicas de ordenación territorial o bien también con razones medioambientales o bien razones urbanísticas y eso es lo que aquí

porque hablan ustedes del comercio minorista y volvemos a estar en la casilla de salida de lo que los tribunales anularon tanto en artículos del plan territorial sectorial como en diversos pronunciamientos y consultas que se han realizado a los tribunales

de la unión europea por lo tanto creemos que esta proposición de ley su bondad si tuviera una y nosotros creemos que una tiene es que nos permite el encauzar el orientar este trabajo de restricción y limitación a través de una ley para las grandes superficies comerciales permite encauzarlo

hemos intentado ese diálogo político yo agradezco a los grupos de la oposición que frenasen lo que era la presentación de esta toma en consideración de la proposición de ley en la cámara hasta que el gobierno se comprometió en su momento a entregar un texto un texto articulado que fue encargado su redacción en el mes de noviembre a juan ramón fernández torres no es un cualquiera sino un catedrático de derecho administrativo un prestigioso y reputado urbanista y por lo tanto

que surge porque en el avance de modificación del plan territorial sectorial se produce la coyuntura de que se nos da a entender

si esa modificación del plan territorial sectorial no acaba siendo una regulación por ley podría ser también anulada en los tribunales y por lo tanto estaríamos ante una inseguridad jurídica más por lo tanto re reconduce el tema por el gobierno vasco

consejero iñaki arriola da cuenta de esta circunstancia en dos ocasiones con motivo de la presentación de los presupuestos dos mil diecinueve y también a raíz de una

y por lo tanto se encarga como digo oficialmente una redacción de un texto articulado que bajo el prisma del máximo consenso que también tuvo aquel plan territorial sectorial algunos de cuyos artículos

del tribunal supremo logremos bajo ese mismo espíritu de amplio consenso y teniendo en cuenta la adaptabilidad necesaria obligatoria impepinable que los criterios de ordenación territorial y los criterios medioambientales

para esas limitaciones y estas restricciones a la implantación o ampliación de grandes superficies comerciales que por cierto tenían que ser además razonadas

razonadas con peso con suficiencia con solvencia

de los datos que proporciona el avance del plan territorial sectorial es por lo que entendemos que el texto articulado que llegando en tiempo y forma por parte del gobierno vasco

entendíamos que ese texto protegía mejor los intereses de ese pequeño comercio de ese comercio minorista que puede ver en peligro digamos su actividad con esa implantación desarmonizada de las grandes superficies en la periferia

por lo tanto por eso apostamos en su momento los socialistas vascos y pretendimos que la oposición entendiese nuestras justificaciones se nos presentó por parte de euskal herria bildu de elkarrekin podemos y del partido popular otro texto en el que incluían esta regulación material que hoy nos traen aquí la volvían en el esquema del texto articulado que nosotros les habíamos planteado con lo cual volvíamos otra vez al inicio de esta digamos de un intento

no se reconocían las inseguridades jurídicas que esta regulación material que tiene la proposición de ley y el texto que en su momento ustedes nos plantearon

volvemos a estar en el desencuentro no obstante yo sí quiero decir y agradecer también al gobierno su digamos predisposición

por responsabilidad en primer lugar porque no valdría cualquier ley ni al gobierno ni a los socialistas vascos les digo desde ahora no nos vale cualquier ley por salvar a lo que es el comercio minoritario o restringir

si no les damos a los ayuntamientos cuya campaña electoral empieza hoy pero hay que decírselo muy clarito si no tienen una ley con máximas seguridades jurídicas pueden verse en el brete de que toda las ciudadanía vasca la guipuzcoana en concreto porque es quien tiene además

hoy en día en la mesa de los arquitectos y urbanistas de los ayuntamientos podamos vernos la ciudadanía vasca en el brete de tener que pagar

muy muy importantes no estamos hablando de pocos euros estamos hablando de muchos miles y de millónes de euros

aquí nos debemos todos una obligación mínima de responsabilidad como parlamentarios que tenemos que dar forma y tenemos que aprobar una ley con las máximas

aquí tenemos que ser todos muy conscientes muy muy conscientes

los socialistas vascos no décimos que el texto articulado que ha presentado el gobierno sea quizás el mejor y el más satisfactorio es el mejor para nosotros ahora que tenemos uno si quizás en este proceso en este digamos ámbito de diálogo técnico que nos hemos dado al acuerdo al que hemos llegado de crear una comisión un grupo de trabajo técnico en cuanto

intentando que esos expertos juristas y urbanistas entendiendo cuál es

que quiere la sociedad vasca entendiendo además cuál es el modelo que compartimos y que consensuamos en su momento en el plan territorial sectorial y cuáles son los artículos anulados entendiendo todo eso ver si esos expertos juristas urbanistas que además tienen la experiencia profesional de verse en los tribunales pueden llegar a un consenso mayoritario que aúne las voluntades mayoritarias de lo que es el parlamentarismo en este caso del parlamento

estoy segura de que ni el texto que ha presentado el gobierno en esta ocasión no va a ser

de consenso pero estoy también cada vez más convencida de que no tendrá nada que ver con lo que es

a la toma en consideración y por lo menos tendremos la seguridad de haber hecho todo lo posible porque tengamos una seguridad jurídica

a los ayuntamientos que tienen en sus planeamientos la obligación legal de asumir las normativas que nosotros pongamos a su disposición podremos decirles que hemos actuado con plena conciencia y responsabilidad para que no tengan

jurídica si tienen que ver estos temas en los tribunales por eso vuelvo a reiterar agradezco al gobierno que no emitiese criterio en su momento ante esta proposición de ley creo que fue un gesto que le honra

querer favorecer un marco de diálogo entre los grupos parlamentarios creo también que es de agradecer señor arriola que llegase

aquel veinte veintiuno de marzo el texto articulado de principio a fin para que nos permitiera el juego del diálogo político

que seamos capaces entre todos los grupos de dar al menos esperar que el grupo de expertos pueda culminar un trabajo que los políticos hemos llegado hasta donde hemos llegado no ha sido posible nosotros les marcamos tres líneas rojas al texto que nos presentó la oposición nos dijeron que no era viables que no entendían las razones que presentábamos para ellos y

se las volveremos a comentar pero entendemos que no ha sido posible llegar en el ámbito de la política a que podamos apoyar esta proposición de ley es verdad hoy se abre un camino a través de la ponencia para enmendar para como digo en primer lugar

plantee un trabajo serio y riguroso y esperemos que con muchas muchas garantías jurídicas y si ese no fuera el caso porque no es viable o porque no se hace factible

los socialistas vascos presentaremos de nuevo nuestro texto el texto que presentaba también el gobierno vasco lo formatearemos a modo de enmienda intentando que a través de las comparecencias que tuvieran lugar en la ponencia pues hacerles ver a ustedes que entiendo que tendrá la mente abierta para hacerles entender y hacerles ver que bueno pues cuanto mayor sea la seguridad jurídica mejor compartimos

parlamentarios un modelo comercial ese modelo comercial que supone que habrá restricciones

superficies en la periferia de las ciudades de las tramas urbanas pero lo que no compartimos es que se eche el cerrojo

a cualquier posibilidad de que una gran superficie se instale en la periferia e incluso en las superficies si tiene más

eso va contra el derecho comunitario contra el derecho estatal

que ya han manifestado la nulidad del plan territorial sectorial anuncio que nos abstendremos para encauzar de nuevo por la vía de ese grupo técnico

un texto que sea de amplio consenso más del que pueda tener esta proposición de ley en el día de hoy gracias eskerrik asko corcuera

una base y con una serie de principios que me gustaría que quedaran

para que a su vez quedara muy clara cuál es nuestra postura entonces de los pronunciamientos jurídicos y judiciales se desprende que primero cualquier restricción a la implantación de grandes establecimientos comerciales debe estar suficientemente motivada

en segundo lugar la introducción de limitaciones superficiales a su implantación no pueden obedecer a razones exclusivamente comerciales

y tercero dichas restricciones deben observar la triple condición de no discriminación

nosotros tenemos claros una serie de principios el primero que el establecimiento de limitaciones sobre el emplazamiento y el tamaño de los grandes establecimientos comerciales

es admisible siempre que se invoquen razones imperiosas de interés general y se acompañen del análisis de su oportunidad y proporcionalidad así como de datos que las corroboren en segundo lugar la introducción de medidas preventivas

para el logro de los objetivos de protección del medio ambiente y la ordenación del territorio tercer principio la integración en un entorno

los efectos sobre el uso de la red viaria y del transporte público y de la variedad de la oferta disponible

criterios lícitos adecuados y proporcionados a los fines de la ordenación del territorio la tutela del medio ambiente y la protección de los consumidores

preservación de la habitabilidad del centro urbano evitando su vaciamiento

o su ejercicio a la aplicación individualizada de una prueba económica o de una demanda en el mercado por lo tanto y resumidamente

salvaguardando la habitabilidad del centro de las ciudades y previniendo la existencia de locales desocupados

dota de justificación objetiva a la interdicción a la prohibición de la implantación de ciertas actividades de comercio minorista en una

de forma que representa una razón imperiosa de interés general legitimadora por tanto estos son los principios sobre los que nosotros

lealmente y profundamente y sólidamente este gobierno son los principios que sustentan la propuesta que ha hecho este gobierno y

a un mínimo espíritu político por el consenso no por la imposición señor casanova de decir

pero por otro lado cerrar las puertas como ha sido su actitud en los últimos meses cambie de actitud si es que quiere un consenso

nosotros lo queremos en beneficio de nuestras ciudades de nuestros municipios y del propio sector creo que tenemos bases creo que tenemos textos si hay un mínimo de espíritu lo lograremos

antes de que termine este periodo de sesiones es decir como máximo en el último pleno del mes de junio el veintisiete de junio

brevemente para puntualizar algunas cosas no voy a entrar en pormenores creo que no es momento de enredar y aquí hay mucho de enredo ha habido mucho de enredo

que se toma en consideración que ustedes votan a favor de una iniciativa que está informada por el gobierno sin seguridad jurídica no iba a ser la primera no iba a ser la primera

su atención en esto porque no es un ejemplo de eso por lo tanto me parece un argumento

no lo han tenido en cuenta solo les digo como dato como dato desde luego desde el grupo popular no llegamos nunca con ánimo de proponer medidas irresponsables y de generar un perjuicio a la ciudadanía y a los ciudadanos vascos ni vascos

a ninguno nunca llegamos con ese propósito y ese no es el propósito por lo tanto no sé por qué hacen mención

aspectos que nadie los ha mencionado y que desde luego no está en nuestro ánimo hablan de consenso y seguridad jurídica mire

hoy se puede recurrir todo otra cosa es

se puede recurrir todo y de eso tenemos ejemplos varios por lo tanto señorías yo creo que es más

voy a ser suave un empecinamiento que

un criterio por lo tanto creo que está bien que lo citen pero creo que ese no es el quid de la cuestión

y poco de objetivo y por lo tanto esa subjetividad

pero desde luego creo que estamos bastante próximos están poniendo el acento en algunos aspectos que ustedes mismos saben que se pueden modular y que todos podemos llegar a un término medio supongo que ustedes también están en esa disposición y el gobierno hizo un gesto porque no le quedaba otra

clara estamos en un momento donde la legislatura

no había oportunidad de introducir un nuevo texto y hemos introducido un nuevo texto que lo aparcamos porque el gobierno

a la hora de ver qué nos proponía el gobierno y hacia donde nos podíamos acercar

ha sido total y nosotros lo que queremos es que salga un texto con el mayor consenso de esta cámara para que nadie lo pueda poner en duda a posteriori eso sí que nos preocupa que tenga el mayor consenso posible

trate de alterar a la primera oportunidad eso nos preocupa mucho y la seguridad jurídica claro que sí yo creo que los tribunales se van pronunciando

cuáles son las directrices y aquello que están

hay cosas que se han ido avanzando pero desde luego creo que la disposición de los grupos

hemos intentado hacer un trabajo constructivo y seguimos en él

gracias señora presidenta brevemente lo que la disposición muestra no es desde luego

a generar ninguna inseguridad ni ningún perjuicio eso que quede claro venimos a contribuir

eso es lo que queremos hacer y queremos que se haga en esta legislatura es lo que no nos perdonaríamos que teniendo la oportunidad no hacerlo eso sí sería un perjuicio

en el turno usted había decidido intervenir en el turno en contra

interviene en el turno de explicación de voto

venir a decir aquí es que entendemos lo que usted deja entrever es que los socialistas vascos

a los pequeños comerciantes de euskadi les hemos dado todas las oportunidades posibles

a sumarse a nuestra iniciativa han pasado cuatro meses

ya se ha explicado de determinadas formas pero ha habido una serie de reuniones y un trabajo para que ustedes vengan a decir ahora que nuestra iniciativa el mayor problema que ustedes le ven

no hay seguridad jurídica no hacer nada eso es lo que de verdad no proporciona seguridad jurídica y lo que no soluciona absolutamente las cosas en cuanto a la seguridad y a la garantía

son anteriores a las últimas las del tribunal de justicia de la unión europea que sí que describe

al que se hace referencia en determinadas prescripciones y que abarca la protección del medioambiente y del entorno

por lo tanto usted está mentando sentencias que son muchísimo más atrasadas que las que están en la actualidad es verdad que no nos vamos a poner de acuerdo

cuál es la iniciativa que nos proporciona mayor seguridad lo que vuelvo a repetir lo que no nos va a proporcionar seguridad es no hacer nada

entonces no tiene las suficientes garantías jurídicas creo

creo que lo que no se puede es apelar a la falta de responsabilidad cuando lo que nos está uniendo aquí

por sacar esta ley con el máximo consenso posible y con todas las aportaciones posibles pero no podemos salir a intervenir diciendo una cosa que no es porque no es de ley usted ha hablado de que no es ninguna broma

y poner en la balanza euros o el planeta que es lo que sostiene la vida y las relaciones sociales y económicas

con consciencia y con responsabilidad esta proposición

de la mano de las comerciantes y de las asociaciones de comerciantes del sector nosotras no tenemos otro interés que no pase por apoyar el tejido local no hay que olvidar que hay otros intereses por encima porque detrás de estos grandes centros comerciales hay muchas veces operaciones puramente

centros comerciales en euskadi son propiedad de grandes empresas multinacional extranjeras y claro también hay que decir que los ayuntamientos regidos en su mayor parte por el partido nacionalistas vasco y por el partido socialista de euskadi

se muestran en desacuerdo no podemos decir una cosa en un sitio y otra en otro en definitiva nosotras ya lo hemos explicado

y se justifica en los motivos de interés general

y además en la práctica se sobreentiende y además usted es consciente de que las sentencias a las que usted apela son anteriores a las que estamos hablando por lo tanto en el mismo tono de construcción en el que hemos trabajado estos cuatro meses que he entendido que no es

en este pleno de verdad es que hay un problema serio vamos a trabajar sin importar quién tiene la iniciativa y quién no porque resulta que los partidos de la oposición tuvieron

al resto de fuerzas políticas para que haya un consenso y sacar adelante una ley que necesitamos que resuelva un problema con respecto a la limitación y ampliación

creo que esto es de lo que tenemos que hablar mila esker eskerrik asko garcía

un pedir que parece un dar vienen desde la minoría a pedir consenso y diálogo y nos ponen poco menos que de inútiles de prepotentes

progresa adecuadamente pero tiene que mejorar oiga por favor un poco de seriedad

incompetencia total y absoluta incapacidad total y absoluta de reparar el roto que por su negligencia previa existía en el sistema de regulación

y no nos venga ahora a decir que no sabemos hacer una ley o que no sabemos dar seguridad jurídica a una ley puede existir efectivamente discrepancia en torno a los criterios jurídicos discrepancia legítima porque

los juristas van a discrepar pero no diga que no tiene seguridad jurídica la ley que traemos aquí tiene la máxima seguridad jurídica posible que nunca es del cien por ciento pero es las máxima porque está basado en sentencias

muy bien estudiada por equipos jurídicos muy potentes y tiene en cuenta la jurisprudencia y la legislación vigentes y es absolutamente rigurosa y por supuesto

porque todas las leyes que afecta a intereses económicos importantes se suelen llevar a los tribunales por parte de un lobby u otro si usted regula a favor del taxi uber le va a llevar a los tribunales y si usted regula a favor de uber

pero que te lleven a los tribunales no significa que los tribunales te lo vayan a tumbar y menos una ley con el rigor que tiene esta porque yo

sé que ella ha trabajado el tema y que ha leído la ley sino diría aquello de que leer sé que se la ha leído pero es que he tenido que volver a releerla

absolutamente experta en la jurisprudencia que ha estudiado hasta la última sentencia

absolutamente rigurosas por parte también de nuestro grupo y de otros grupos y aquí hay abogados y aquí hay arquitectos y aquí hay urbanistas y aquí hay juristas otra cosa es que se pueda discrepar también entre expertos eso no se lo niego y yo eso no se lo voy a poner en cuestión su derecho a tener otra perspectiva jurídica pero a minusvalorar y a rebajar la calidad técnica de las cosas que hacen otros pues no hemos venido desde luego eta

y voy a terminar también con otra frase de churchill yo voy a dejar los agradecimiento más efusivos

pero decía aquello de la batalla de inglaterra y ahí pronunció en ese contexto otra frase que es aquella de

fuerza aérea pues yo en este caso también quiero decir que si estamos aquí donde estamos es gracias fundamentalmente al impulso de un grupo de comerciantes

que han tenido la perseverancia y la capacidad de meternos a todos los partidos en harina

vuelvo a repetir si actuáramos con las tripas de verdad yo es que aquí terminaba el proceso de diálogo se aprobaba la ley tal y como está y se acabó

a actuar con la cabeza a actuar en beneficio del bien común a dejarnos cada uno sus sentimientos un poco aparte y a ser racionales y desde esa racionalidad vuelvo a repetir que estamos dispuestos al diálogo a las mejoras técnicas y jurídicas que otros grupos estén dispuestos a aportar

que las vamos a escuchar y las vamos a valorar con la máxima seriedad porque ayer ya desmontamos aquello en términos cuantitativos aquello de la pinza que algunos están tratando decir y demostramos que las alianzas generales van en otro sentido

con el partido popular precisamente es el gobierno pero hoy también de forma práctica estamos desmontando esa cuestión hemos aprobado una ley porque se ha dialogado y porque se ha negociado y porque no tenemos ningún empacho en aprobarla hoy euskal herria bildu

porque entiende que políticamente es así pero no estamos destruyendo ni obstaculizando ni poniendo palos en la rueda del gobierno estamos

de un gobierno que muchas veces no está donde tiene que estar y es la oposición la que tiene que cumplir responsabilidades que debería el gobierno haber zanjado hace mucho tiempo eskerrik asko

a favor de esta proposición de ley y por lo tanto estoy en mi derecho si no la presidenta me hubiera quitado la palabra en segundo

no es esta parlamentaria quien realmente ha puesto en el brete digamos la actitud que ha tenido el gobierno en esta cuestión ha sido usted señora garcía quien ha dicho y ha hablado de pasividad y lentitud en legislar el gobierno inacción premeditada del gobierno vasco hemos tenido suficiente paciencia y es una proposición de ley magnifica mire yo a la asociación de comerciantes o a las federaciones mi máximo respeto nada que decir

toda la responsabilidad que puedan tener en este acto

señor casanova en primer lugar no estamos aprobando ninguna ley estamos en la toma en consideración de una proposición de ley que inicia un camino en una ponencia y que saben ustedes como nosotros que esta no puede ser la proposición ni la ley que va a acabar en este parlamento ustedes

y si no lo saben y si no quieren porque han decidido que este es el camino en fin debemos de hablar con las tripas mire la lengua con ampollas de mordérmela precisamente para lograr la posibilidad de acordar y de un consenso

de intentar hablar con la presentación de un texto articulado ustedes hablaban de desconfianza

esta humilde parlamentaria qué les decía ojo

de responsabilidad porque hay informes jurídicos serios potentes rigurosos que vienen a decir que si hay reclamaciones jurídicas

artículos que han sido anulados porque hay sentencias que están diciéndonos que efectivamente si vamos por el camino de hablar del comercio minorista

como algo fundamental para que nosotros establezcamos limitaciones

tenemos las de perder y no nosotros tendrán las de perder los ayuntamientos

tengan sus alcaldías ya restablecidas podrán encontrarse con una ley que les va a hacer mucha mucha pupa porque habrá reclamaciones económicas

no ya de miles de euros millónarias ustedes saben que hay hoy en el gobierno vasco reclamaciones de muchos millónes de euros por lucro cesante

importantes que no es que nos vayan a llevar a los tribunales evidentemente no hay un cien por ciento de certeza jurídica pero sabemos que van a recurrir con qué vamos con qué vamos con un texto qué sabemos que está mal desde el principio desde el título o vamos con algo más serio

lo que son las máximas seguridades y certezas jurídicas teniendo en cuenta las sentencias los pesos de profesionales que están trabajando en materia urbanística y en materia del derecho que conocen perfectamente cual es digamos la normativa europea

supremo queremos eso o no queremos queremos eso o no queremos bueno pues los socialistas sí queremos

de intentar que una comisión técnica llegara a ese tipo

concentrar consensuar una propuesta de texto articulado que nos eliminara al máximo posible las dudas

a los juristas que hayan trabajado la propuesta de la proposición de ley no significa que vayamos en contra

significa que porque queremos que el comercio minorista tenga un futuro tenemos también no podemos dejar en la cuneta apartados a los ayuntamientos con una ley que sabemos desde el inicio que les va a hacer mucho

seremos la ciudadanía vasca seremos las ciudadanas de donostia san sebastián seremos la ciudadanía de eibar será la ciudadanía de irun

quien a través de nuestros impuestos tendremos que pagar esas reclamaciones y eso va a ser sí o sí lo podemos atemperar lo podemos minorizar o lo podemos dejar

en los tribunales y nosotros entendemos como decía el señor casanova en un artículo que lideraba

lo mejor es llegar a un acuerdo unánime y aprobar una ley que limite la implantación

en esas estamos en esas señor casanova usted sabe que a mí me va a encontrar en llegar a un acuerdo pero un acuerdo responsable y con las máximas seguridades jurídicas lo dije desde el primer día que me reuní con todos ustedes y lo seguiré diciendo hasta el final

que la próxima ley que traigamos la ley que sea para aprobar de verdad sea para que esos señores tengan un futuro y para que los ayuntamientos no se vean abocados

no era mi intención la de hacer alusión a la pinza

el grupo parlamentario del pnv pueda coincidir con ustedes o pueda coincidir con el partido popular o con podemos

quienes coinciden son ustedes y el partido popular después de decirse lo que se dicen y calificarse como se califican y no voy a traer

aquí a colación por ejemplo las declaraciones del señor alonso con todo respeto después de

bueno esa es la pinza de posiciones tan distantes sí ahora venga sí

no es su turno tan distantes y después de decirse lo que se dicen pero bueno yo

camino londres intentando sustituir a la señora may al frente del partido conservador

tanto citar y tanto leer biografías de churchill y sus citas verdad señora ubera pues al final parece que se le va a pegar

esa disposición no había escuchado esa disposición a negociar

y a recibir propuestas no lo había escuchado y me parece que en fin es un poco de sí vamos allá pero ojo cerrada la puerta un poquito la señora corcuera yo creo que lo ha descrito

nosotros lo que décimos es que el gobierno no solo ha cumplido su palabra en términos de calendario con respecto a la oposición presentó los informes que precisamente eso presentó los informes es decir no solo presentó un texto articulado

pero los presentó no hemos visto por su parte ningún tipo de informe

a la proposición de ley que han presentado y algunas argumentaciones jurídicas se las hemos pedido vamos a ver si en el trámite de ponencias sí señora ubera

una serie de informes simplemente para contrastar y analizar

será la palabra de uno contra la del otro pero bueno el gobierno al menos ha cumplido su palabra ha hecho sus deberes y tiene una serie de informes que acompañan a su texto articulado eso a nosotros nos da seguridad y creo que al sector también

en pura reciprocidad y justa reciprocidad pedimos

nosotros también reiteramos y yo creo que la señora corcuera lo ha dicho en sus dos intervenciones yo creo que sería importante porque evidentemente seguro aquí cien por ciento

pero que los expertos juristas urbanistas

y a ver si consiguen limar esas tres cuestiones que son digamos el nudo gordiano de las diferencias que mantenemos y nada más y reiterar

como máximo el último pleno del mes de junio para la cual tiene que presentar algún cronograma

de eso ya hemos hablado también no le hemos visto todavía y

y que efectivamente tengamos la ley antes de que finalice este periodo de sesiones eskerrik asko eskerrik asko

pero más allá de promesas queremos reiterar nuestros compromisos de tratar de articular esas reivindicaciones

para mejorar las condiciones de vida de las personas mayores y pensionistas y es precisamente en ese compromiso continuo que tenemos con las personas pensionistas donde hay que situar

justuki sexu bazterketaz aritzen dena además los recortes y reformas que se han dado en el sistema de pensiones han afectado de manera significativa a las mujeres los datos los conocemos y son brutales ciento treinta y tres mil mujeres pensionistas frente a los doscientos veintitrés mil mil quinientos sesenta y ocho euros de pensión media para un hombre

seiscientos sesenta y uno euros de diferencia son ellas las que perciben las pensiones más bajas

emakumeak datos que reflejan la realidad de miles de mujeres

sus trabajos en los sectores en los que se daba de alta a los hombres en los que las mujeres no tuvieron acceso a sectores de empleo de calidad

y de las que tenían que dejar el trabajo para casarse mujeres que sufrieron

condenados a los cuidados como ya dijimos una vez por una concepción de lo que eran sus obligaciones

egoera horiek zuzentzeko toca reparar y compensar a estas mujeres que han sostenido la vida que sostienen la vida

establecer nuevos equilibrios y poner a las personas a estas mujeres en concreto en el centro de las políticas públicas en la línea de un acuerdo que este

el pasado dieciocho de octubre un acuerdo al que llegamos con el partido nacionalista vasco y el partido socialista

popular y esta iniciativa que traemos hoy lo que pretende es precisamente avanzar dar un primer paso en ese plan de compensación específico que acordamos poner en marcha

tresna potentea eta erabat gure esku dagoena una herramienta potente que está en nuestra mano pero que presenta una serie

de género y que genera además desigualdades que nosotras consideramos que es imprescindible corregir printzipioz eta definizioz indibiduala den diru sarrerak bermatzeko errentaren

es vital en el caso de las mujeres y sobre todo para mejorar las condiciones de vida de aquellas que habiéndose dedicado a los cuidados se ven viviendo con pensiones muy bajas o sin pensiones y sobre todo es una herramienta muy útil para compensar

con las pensiones sonia carrasco profesora del departamento de economía aplicada de la upv y autora de un estudio sobre la realidad de las mujeres en situación riesgo de exclusión social

que ha estudiado además y que ha analizado en profundidad nuestro sistema de prestaciones desde la perspectiva de género entre sus recomendaciones recomendaba precisamente

y es precisamente para acabar con ese tipo de desajustes ese tipo de injusticias en materia de género

por las que euskal herria bildu considera urgente iniciar un proceso para hacer uso del derecho de la renta de garantía de ingresos como un derecho de carácter para mejorar entre otras las condiciones de vida de las mujeres pensionistas con pensiones más bajas eta hori da zehazki legez besteko proposamen honetan

que se iniciaría con un estudio en profundidad de las situaciones de vulnerabilidad que pueden darse en las unidades de convivencia de los beneficiarios de la renta de garantía de ingresos porque es verdad

en el que se analizaría específicamente la situación de esas situaciones de vulnerabilidad pero que pueden tener las mujeres en general pero en especial aquellas

también las situaciones que se dan en aquellas unidades de convivencia contempladas como excepcionales y un estudio además en el que se buscarían vías para acabar con esas situaciones de dependencia económica respecto de sus parejas que viven aquellas mujeres en situación de vulnerabilidad con pensiones más bajas un proceso que continuaría con la presentación de una propuesta

requeriría y por último establecería la dotación económica correspondiente

iniciativa va a tener recorrido los grupos que sostienen al gobierno vuelven con una enmienda que bien podría llevar ese sello de preocupados y confiados que comentaba el otro día el señor

que se hicieran acuerdos o se hicieran propuestas responsables no sé si esta materia no requiere algún tipo

debatimos una iniciativa del grupo eh bildu sobre el ejercicio como un derecho de carácter individual de la renta de garantía de ingresos por parte de mujeres pensionistas que viven con pensiones bajas y sinceramente señora

sorprendida con esta iniciativa contamos en la actualidad

el mejor de todas las comunidades autónomas que surgió fruto de un proceso de tramitación de una ley dentro de nuestro parlamento vasco y que contó con un amplio consenso

y a la vez sea sostenible en el tiempo la ley dieciocho barra dos mil ocho de veintitrés de diciembre para la garantía de ingresos y para la inclusión social regula dos elementos claves en el acceso al ejercicio del derecho

por vivienda o alojamiento y por otro la unidad de convivencia la unidad de convivencia constituye lógicamente uno de los componentes esenciales del modelo

de cada una de las prestaciones su nueva delimitación en el año dos mil ocho pretendía dar respuesta a situaciones particulares que habían causado importantes dificultades

de la normativa anteriormente vigente y lo hacía mediante dos elementos de innovación complementarios se proponía una modificación que supone un claro avance hacia la universalización del modelo consistente básicamente en considerar unidades convivenciales

junto con las personas que dependan económicamente de ellas

a las prestaciones de personas que aparentan el cumplimiento formal de los requisitos exigidos para la constitución

esta iniciativa pretende cargarse el sistema recogido dentro de la misma y propone basarse en un derecho estrictamente individual

el concepto de unidad de convivencia y no podemos intentar cambiar todo el sistema regulado en una ley trabajado como he dicho en un amplio consenso si no es en su conjunto en esta línea se inició por el gobierno vasco un borrador de proyecto de ley para la garantía de ingresos y para la inclusión social en junio del dos mil dieciocho se consideró por parte del grupo

con mayor celeridad y que su aprobación pudiera estar finalizada antes de finales del dos mil dieciocho se presentó ante este parlamento como una proposición de ley

buscar un consenso con los diferentes grupos parlamentarios durante este último año y no ha sido posible dentro de este proyecto de reforma había modificaciones importantes diferenciar la renta de garantía de ingresos de la renta de garantía de pensionistas recoger complementos a abonar que incrementan la cuantía de la renta de

existentes en la unidad de convivencia si existía algún miembro en la unidad que tuviera

o era víctima de violencia de género entre otros establecía mejoras importantes que evitaban exclusiones que en la actualidad se producen con las segundas viviendas y que están siendo perjudiciales en muchos casos para los ciudadanos de esta comunidad autónoma vasca es curioso que el grupo proponente de esta iniciativa no ha querido profundizar para poder llegar a acordar esta reforma retrasando por tanto el proceso alargándola en el tiempo

a nuestro juicio de todos los ciudadanos en especial de los más necesitados aquellos más vulnerables al impacto de la pobreza y la exclusión social

hoy viene aquí y propone modificar todo el sistema de garantía de ingreso existentes no por una ley del consenso de esta cámara no por una proposición no de ley pues mi grupo parlamentario los socialistas vascos no podemos estar de acuerdo

para cambiar la renta de garantía de ingresos a un derecho individual de modo que entre en vigor para el uno de julio del dos mil diecinueve

se traigan además antes todas las propuestas de modificación legales necesarias es decir todo esto se propone en tres meses y yo me pregunto

creen que se puede cambiar tan frívolamente todo el sistema de garantía de ingresos un sistema que está considerado el mejor de españa y uno de los mejores de europa de esta forma una de las razones que argumentaba el grupo proponente para no entrar al acuerdo del texto de proposición de ley garantía de ingresos y para la inclusión era el que haberse presentado por esta vía se carecía de los informes que el grupo proponente le daba mucha

y que se tendrían que haber acompañado en el caso de que se hubiera tramitado por la vía de proyecto de ley por el gobierno yo les pregunto ahora

y que pretende un cambio del sistema de garantía de ingresos sin ningún debate en esta cámara tiene va acompañada de algún tipo de informe

no se puede intentar modificar a nuestro juicio a juicio del grupo parlamentario socialista un sistema de renta de garantía de ingresos a golpe de impulsos hoy propongo cambiar un colectivo

cambiar otro colectivo hoy tenemos unidades de convivencia mañana quiero que se apliquen para algunos derechos individuales para otros otra cosa pues

realizar de esta forma el sistema de garantía de ingresos ha de intentar modificarse para mejorarlo nunca para empeorarlo y desde luego

que es lo único que garantiza la igualdad de trato de todos los ciudadanos que cumplen los requisitos exigidos para ejercer ese derecho subjetivo reconocido

transaccional con el grupo proponente porque no estamos en absoluto de acuerdo con el cambio que se propone dentro de la misma que lejos de mejorar empeora el sistema de garantía de ingresos y que ustedes han presentado sin contar

de estudio de consenso ni de nada no tienen ni idea del impacto que tendría en el sistema dicha modificación ustedes lo proponen que el gobierno en el plazo de tres meses haga los estudios que sean necesarios la presente

mi grupo parlamentario los socialistas vascos tenemos responsabilidad de estado y estamos dispuestos a trabajar para dar estabilidad

para trabajar en la mejora del sistema de garantía de ingresos en todo lo que haga falta pero nunca nos encontrará apoyando medidas que puedan desestabilizar el sistema que carecen de todo tipo de apoyo y soporte técnico por eso vamos a apoyar nuestra enmienda a la totalidad la enmienda presentada por el grupo nacionalista vasco socialista el resto de los grupos de la cámara no han presentado enmiendas a la totalidad espero que el resto de los grupos no hayan presentado esta enmienda de la totalidad porque no están de acuerdo con la iniciativa presentada no entenderíamos
otro planteamiento nada más muchas gracias eskerrik asko sánchez

de la ley para la garantía de ingresos y para la inclusión social que como todos ustedes saben está vigente desde el dos mil ocho y se modificó algunos

año dos mil once personas titulares destinatarias y preceptoras personas titulares

ocho de la ley para la garantía de ingresos y para la inclusión social señala que son titulares de las prestaciones económicas las personas a nombre

el derecho personas destinatarias las personas que forman parte de la unidad de convivencia y personas perceptoras con carácter general las personas perceptoras

económicas de derecho las personas titulares de las mismas con aquellas excepciones que se establezcan reglamentariamente el artículo nueve como todos ustedes saben se refiere

configura la renta de garantía de ingresos como un derecho subjetivo

que cumplan los requisitos específicamente regulados para el acceso a la prestación en la modalidad que resulte de aplicación es decir la renta de garantía de ingresos porque así fue la voluntad del legislador se constituyó como un derecho subjetivo

uno tiene a tal derecho siempre que se cumplan una serie de requisitos

en el artículo dieciséis mejor dicho quiénes son titulares del derecho cumpliendo esos requisitos que legalmente están establecidos como son constituir una unidad de convivencia

anterioridad tener un empadronamiento previo y una residencia efectiva no disponer de recursos suficientes y también ser mayor de veintitrés años salvo algunas excepciones también que están establecidas legalmente por lo tanto estamos ante un derecho subjetivo iba a decir que estamos ante un derecho individual otra cuestión que es lo que creo que es el objetivo de la iniciativa presentada por el grupo

es cómo se quiere hacer el cálculo de ese derecho que se hace en relación a los miembros de la unidad de convivencia

es que ese cálculo tenga en cuenta a cada uno de los miembros de la unidad de convivencia y se reconozca en consecuencia un derecho con cada miembro de la unidad de convivencia cuestión

pero el derecho subjetivo está ahí y el derecho subjetivo corresponde a aquellos como he dicho que cumplan los requisitos

proiektu bat bidaliko zela legebiltzarrera yo creo que sería más adecuado y dado que hay en tramitación una

en la tramitación correspondiente sí que es cierto que a día de hoy no tenemos una normativa vigente

que se haya modificado a lo largo de esta legislatura

reformas la reforma de la normativa de la renta de garantía de ingresos del sistema de ayudas sociales y la reforma de lanbide como

a iniciativas iniciativas y muchas de ellas eran iniciativas que se repetían en el tiempo y en los periodos de sesiones porque entendíamos que el gobierno no avanzaba

ya planteamos modificaciones concretas para

cambios que eran absolutamente necesarios y que en un principio el gobierno en la pasada legislatura los negaba y que luego yo creo que ante la evidencia de los hechos y de los datos

más remedio que reconocer que eran necesarios cambios en los dos ámbitos y tanto es así que en esta legislatura

dentro de los principales retos en el departamento y en las políticas sociales del gobierno ha sido

y la reforma de la renta de garantía de ingresos nosotros queremos lamentar nuevamente que transcurridos casi tres años de legislatura no haya un texto no tengamos modificación ya aprobada en esta cámara sí que es cierto que como bien se ha dicho aquí se presentó por parte de los grupos que apoyan al gobierno el veintitrés

aipatu genuen por eso hablamos del incumplimiento de los compromisos del gobierno en relación a los compromisos adquiridos como decía

este proyecto en el primer cuatrimestre del dos mil dieciocho sí que es cierto que luego en una iniciativa

en una enmienda de transacción suscrita a propósito de una iniciativa del grupo popular

a tres meses nosotros entendemos y volvemos a reiterar lo que habido dejación de la responsabilidad de este gobierno

esta proposición de ley y entendemos también como ya lo dijimos en su momento que el instrumento era absolutamente inadecuado obviamente un proyecto de ley la acompañan una serie de informes preceptivos que informan sobre una serie de cuestiones

de la valoración económica del impacto económico otra serie de cuestiones el informe de la cojua que son

entendimos que no se había alcanzado el consenso necesario para tramitar esa iniciativa

de cara al futuro pues yo creo que es responsabilidad del gobierno intentar desatascar estas cuestiones y

lo haga porque entendemos desde el grupo popular que obviamente la gestión de las ayudas sociales es manifiestamente mejorable y por otra parte que lanbide realmente

que tiene asignados en la propia legislación y es un instrumento específico puesto al servicio de la ciudadanía vasca y lamentablemente no está funcionando en los mismos pero vuelvo a insistir eta bukatzen dut

nuestro grupo parlamentario en elkarrekin podemos apostamos por un horizonte de renta básica incondicional y que también somos muy críticas con la actual renta de garantía de ingresos

el camino de la condicionalidad no es nunca un paso previo a la incondicionalidad y la verdad es que es un tema súper interesante que daría para un monográfico pero no se preocupe nadie que no estoy proponiendo uno lo que sí tengo claro es que sea o no sea el camino que hemos elegido mi camino favorito los caminos se hacen andando como en su día dijera machado al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar

dugularik en ese camino como decía es importante volver la vista atrás y conocer qué es lo que ha pasado en este tiempo diciembre de dos mil dieciséis

del partido popular que quiso dejar clara cuál iba a ser su postura

una postura que hoy vemos descafeinada pero que se reduce a recortes y criminalización se llega a un acuerdo cuatro de las cinco fuerzas de esta casa para una reforma de consenso en el mientras van pasando distintas cosas

esa reforma de lanbide cuestión que seguimos esperando y que lleva ya la friolera de un año y cinco meses de retraso también a propuesta del elkarrekin podemos nos comprometemos a modificar cuestiones en etxebide para dotar de coherencia a las políticas de vivienda y de garantía de ingresos seguimos esperando

a propuesta de nuestro grupo y justo casualidad en el previo a una interpelación a la sailburu para verificar el cumplimiento de dicho compromiso nos encontramos

eso sí un documento descafeinado de criterios que no sirve porque en lanbide siguen aplicando cosas que no se explican en ninguna parte se acordó traer también un documento de reforma de la rgi un poco tarde pero ese sí llegó

sola de las cuestiones planteadas en toda y cada una de las comparecencias que se han producido a lo largo del dos mil dieciocho se acordó también

de los focos del electoralismo y nos encontramos con que a pesar de que el estudio previo lo pagamos todas y lo hace pricewaterhousecoopers lo presentan

en junio del año pasado teníamos que haber abordado ese debate sobre una propuesta que no cumplía ni una sola de las condiciones planteadas en los distintos acuerdos ni una

reconocido en euskadi una propuesta profundamente estigmatizadora y criminalizadora de la pobreza y de las personas empobrecidas una propuesta que podría haber presentado perfectamente el partido popular pero que ni al partido popular le gusta

y que a día de hoy está bloqueando un tema crucial en este parlamento total que estamos en mayo de dos mil diecinueve y seguimos igual que en diciembre de dos mil dieciséis pero con un montón de carpetas en nuestros despachos y sobre todo

porque oyen tambores de recortes pero no terminan de saber cuándo ni por dónde les van a llegar

una iniciativa coherente con la estrategia política de bildu y en todo caso coincidente con la voluntad de elkarrekin podemos en la necesidad de ampliar y ensanchar el derecho a la garantía de ingresos

lamentablemente esto tampoco va a ir a ningún lado porque donde unos dicen diego

una vergüenza pero sobre todas las cosas me provoca muchísima tristeza porque si alguien escucha esta relación de hechos qué va a pensar nada menos que llevan dos años y medio jugando con la gente que llevamos dos años y medio incumpliendo

que la clase política solo acuerda para determinadas cosas

y es que no tiene sentido no tiene sentido que estando asumido y compartido por todos los grupos políticos

a tener unos ingresos mínimos no funciona no tiene sentido que asumiendo todas que no funciona no se ponga remedio porque si no se dan cuenta

desprotección de personas en situación de pobreza desprotección de niños y niñas cuyas familias no cuentan hoy con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades vulneración de derechos de personas mayores y pensionistas

desde que borja belandia asuma el timón de lanbide con la dirección de la señora artolazabal han bajado sí pero sabemos cómo resulta que lanbide no registra si han bajado porque han accedido o no a un empleo lo que sí sabemos es que de media cada mes

pierden la prestación sabemos que de las miles de rgi que se han suspendido

menos ingresos de los que consideramos mínimos para hacer frente a una vida digna y nada

que presentemos las demás señoras y señores de los partidos que sustentan al gobierno ustedes

y lo están haciendo porque da la sensación de que ponen por delante los intereses del partido del gobierno no lo sé pero desde luego no los de la ciudadanía y eso nos parece feo vuelvo a la iniciativa que hoy se debate individualización de la prestación sí sin duda

porque desde que nos presentamos a las elecciones que nos trajeron aquí defendemos esa posibilidad y nosotras somos coherentes gure bi mila hamaseiko programa jada defendatzen genuen

en primer lugar porque las mujeres son las principales perjudicadas del sistema de las unidades de convivencia y eliminarlas planteando la rgi un derecho de las personas y no de la familia a esa igualdad y en especial ayudaría a cambiar el rostro de mujer pensionista que tiene la pobreza en euskadi pero también porque sería una solución adecuada y proporcionada para solventar gran parte de los problemas que hoy tiene lanbide para calcular las rgi en relación a las unidades de convivencia

es justo lo contrario a la propuesta absurda que proponen el pnv y el pse

tienen que compartir los ingresos y cobrar todas juntas aunque no compartan ni la sal de las comidas también porque es una realidad en euskadi que el precio de la vivienda impide que muchas familias en situación de precariedad o pobreza accedan en solitario a una vivienda

eso pasa y porque es una realidad que la pobreza atraviesa a las distintas personas de distintos modos y es indispensable atender de forma individualizada

y nuestros planes pero sobre todo porque esto es un derecho subjetivo de las personas en euskadi a contar con unos ingresos suficientes y mediante la individualización daríamos un paso de gigante en ese objetivo porque a día de hoy tenemos una prestación

y eso no se nos puede perder del foco dicho esto podemos tener diferencias y coincidencias podemos tener diferencias en si el camino para llegar haciendo la individualización de forma preferente o prioritaria con personas con dependencia discapacidad personas mayores previsión de las mujeres pensionistas

el camino que elegiríamos pero lo que no tenemos duda es que el estudio que pide el primer punto supondría un avance un paso en el camino que tenemos la obligación de recorrer

derechos en euskadi y sería sin duda un reconocimiento claro al sufrimiento de las personas que se encuentran en situación de pobreza gizarte eskubideen

apoyar la proposición de eh bildu y vamos a seguir trabajando

porque como decía machado el camino se hace al andar paralizados no caminamos besterik ez eskerrik asko

es usted un partido de estado decía ustedes piden seriedad con las cosas con seriedad nos dicen no han presentado ustedes informes no sé qué una propuesta cómo han presentado ustedes la suya señora sánchez y están ustedes en el gobierno cómo está presentada qué informes tiene su propuesta tiene memoria económica tiene informe de género

con respecto a otro tema también me gustaría recordarle

en el pleno de política general un pleno en el que idoia mendia daba las gracias a eh bildu por no haber cerrado la puerta a esta propuesta

eso lo dijo idoia mendia en esta cámara

esaten zuen entre la definición de la unidad de convivencia y la protección a los miembros que constituyen

señora kortajarena usted ponía en valor

hemos estado intentando llegar a un acuerdo de la proposición de ley para la reforma de la renta de garantía de ingresos su grupo parlamentario ponía en valor que la reforma del sistema de la renta de garantía de ingresos se tenía que hacer buscando el mayor consenso posible entre grupos

con una propuesta que pretende un cambio absoluto dentro del sistema que mezcla cuestiones de pensionistas con rentas de garantías de ingresos que pide un derecho individual

que existe y que da estabilidad al sistema de garantía de ingresos y le da lo mismo y a nosotros esto hemos dicho que no nos parece serio y usted ha dicho que en todo este tiempo

yo creo que no y yo creo que nosotros hemos participado

se ha intentado por activa y por pasiva pero nosotros los muros los hemos visto en el lado contrario nosotros hemos visto todo el rato un muro que ha sido imposible salvar y

es que si ustedes tampoco estaban dispuestos a entrar a negociar seriamente

hace un año decir pues no queremos entrar a negociar cuando en el pleno que tuvimos aquí para devolver la proposicion de ley al gobierno se pidió que se quería más tiempo para negociar pero al final no hemos visto una

intención de llegar un verdadero esfuerzo para intentar negociar el mismo estamos donde estamos ahora mismo y hemos perdido todo este tiempo pero cada uno tiene que asumir sus responsabilidades porque no es responsabilidad del gobierno y del grupo parlamentario

un año intentar llegar a ese acuerdo que ha sido absolutamente imposible y durante el mismo algún grupo

a un acuerdo como ha sido el grupo popular luego por otro lado he dicho

de ley se diferenciaba entre renta de garantía de ingresos y renta de garantía de pensionistas ya se establecía una individualización dentro del mismo y ahora

que era positiva y que iba en la línea de lo que están planteando aquí pero no como no se ha entrado a ahí pues eso no ha podido

se seguirá como proyecto de ley pero desde luego como hemos dicho se ha intentado hacer lo más rápido posible pero no es culpa del gobierno

del grupo parlamentario socialista el haber perdido todo este tiempo hemos intentado negociar no se ha podido llegar a un acuerdo en ese sentido señora guanche

no estamos hablando de renta universal evidentemente

completamente distintas en la renta de garantía de ingresos se tiene que cumplir unos requisitos y las personas que cumplen esos requisitos tienen derecho a acceder a la misma y además dentro de la iniciativa planteada se presenta como que existe una diferenciación o una preferencia y que da una prioridad la renta de garantía de ingresos a los hombres

establece una diferenciación en ese sentido dentro de las unidades de convivencia porque

puede ser un hombre o puede ser una mujer el que lo pida y el resto serán

se tendrán en cuenta y se sumarán dentro de la unidad de convivencia es lo que está establecido desde luego a nosotros no nos parecía serio el presentar hoy

no hemos querido llevar a cabo una enmienda transaccional en este sentido sino que queremos que se efectúe una reforma de la renta de garantía de ingresos seria estudiada como un todo y que además dé estabilidad a un sistema de garantía de ingresos que es ejemplo en españa y también ejemplo

para que el poeta no tenga que decir caminante no hay se hace camino al andar empecemos por lo que decía el poema hace algún tiempo en este lugar donde

se oyó la voz de un poeta gritar caminante no hay camino se hace camino al andar presidentearen baimenagaz nire azken

bultzatuta eta ganbara honetan ganbara honetan esto ha sido un bosque y mi deseo es

que nos impidan andar y que impidan andar a los siguientes caminantes en la construcción de este país estoy segura de que todos y todas nosotras

y no deberíamos dar pasos en ese sentido porque a veces forzamos mucho los discursos tal vez para pronunciar no sé

no tengan espacio y puedan encontrarse por eso insisto creo que es muy importante la parte de ese poema que tal vez se recuerda menos que aquí nadie diga que un momento hubo bosque y ahora hay espinos bederatzi urte

me gustaría una cosa y es que si algún día nos encontramos en el camino en un camino político en uno personal si nos encontramos en la calle que es probable todos y todas nos podamos mirar a la cara que me pueda mirar con ustedes a la cara

le deseamos lo mejor sin duda hemos compartido pues muchos momentos y en muchas comisiones

generación somos también mujeres con unas preocupaciones también específicas y

espacios de encuentro también hemos debatido

con mucha fogosidad y bueno yo también quería

el reconocimiento y creo que también por su parte ha sido así o sea que en ese sentido desde el grupo popular le deseamos lo mejor en su nueva andadura

hay que decir que de forma clara y rotunda y porque así lo dice la ley

es que las cuantías que corresponden a la unidad de convivencia se calculen

de acuerdo a los miembros de la unidad de convivencia y se tienen en cuenta los miembros de una unidad de convivencia indudablemente para el cálculo de dicha

poder conocer su propuesta con una mayor precisión conocer el impacto

por lo menos si no lo recogía en el texto escrito sí que aquí hubiéramos tenido ocasión de conocer en sus afirmaciones

por finalizar dos referencias yo creo que son distintas y se ha dicho también aquí una cosa es hablar del sistema de ayudas sociales y otra cosa es hablar del sistema de pensiones el sistema de ayudas sociales

a una serie de colectivos entre los que hemos considerado que estén incluidos los pensionistas pero no es un sistema de pensiones que por cierto señora kortajarena en euskadi sería absolutamente inviable

de euros anuales que hacen absolutamente inviable tener un sistema de pensiones propio

otra referencia precisamente la preocupación de los gobiernos del partido popular donde ha habido competencia en la materia precisamente ha sido incrementar las pensiones

presupuestario pero esas cuantías fueron recogidas en el presupuesto precisamente en el presupuesto que ha ejecutado

de las pensiones de viudedad y de las pensiones de jubilación por no recordar también el complemento de pensiones

que han sido madres en función del número de hijos en un quince por ciento y ese es el camino y creo que también es importante que ese pueda ser el camino siempre que las condiciones permitan incrementar el empleo que es la mejor política social y para acabar señora sánchez le tengo que hacer una referencia mire la propuesta que hicieron los grupos y además vino firmada por usted como representante del partido socialista

nosotros la consideramos una tomadura de pelo a este parlamento porque además fue presentada en el momento en que este agrupación hizo interpelación a la consejera sobre ese asunto

cuando la responsabilidad correspondía al gobierno correspondía al gobierno porque el gobierno en su calendario legislativo tenía el compromiso de remitir a esta cámara un proyecto de ley

va acompañado de todos esos documentos que son absolutamente necesarios para estudiar de una forma más exhaustiva un texto legal

nosotros todavía estamos esperando porque hemos considerado insuficiente la información y la documentación que nos ha presentado hasta este momento nosotros hemos pedido en un texto en el que hay sesenta y ocho remisiones reglamentarias y en el que se nos ha dicho que ya se estaba trabajando en los decretos puesto que no tenemos

decretos queríamos saber en lo que se estaba avanzando para conocer

de la ley porque era un texto absolutamente impreciso absolutamente abierto si es que ustedes han planteado un texto

les sirve para pactar con todo el mundo porque no hay precisiones no hay exactitudes que ustedes las fían a un futuro desarrollo reglamentario por lo tanto ustedes asuman su responsabilidad

absolutamente constructiva pero ustedes desde el momento sus responsabilidad y obviamente si no han traído un proyecto de ley con una serie

queremos trabajar para modificar la legislación vigente y la reforma de lanbide que son nuestros objetivos pero no ya desde esta legislatura

desde la legislatura pasada que como usted bien sabe se plantearon dos reformas concretas que ni siquiera se tomaron en consideración en esta cámara eskerrik asko

la primera es que efectivamente el derecho subjetivo reconocido a la garantía de ingreso

individual y tenemos tenemos un buen sistema de base pero la proposición de ley que se ha traído a esta cámara supone en rebajar en mucho esa buena proposición de base y lo hemos dicho por activa y por pasiva en múltiples

para dar pasos atrás no señora sánchez nosotras no mareamos somos claras escuchamos a la gente experta escuchamos a la gente preceptora

y no en el presupuesto y la sensación que tenemos es de que este proceso de reforma se está convirtiendo con el tiempo en

intentando repetirlo no somos responsables desde la oposición ni de los incumplimientos ni de los fracasos ni de la sordera de este gobierno solo faltaba con lo suyo yo asumo mi responsabilidad elkarrekin podemos asume su responsabilidad pero por favor cada uno a sus cositas tercera cosa

ustedes usted ha dicho si no le he entendido mal que la proposición de ley que han presentado el pnv y el pse establece la individualización de la prestación

y eso no es así las separa de la renta de garantía de ingreso general

porque la renta de garantía de ingresos para pensionistas parte de la misma base precaria que dice que en euskadi con cuatrocientos cincuenta y cinco euros se tiene que vivir con suficiencia de ingresos y luego sigue acumulando a los pensionistas en unidades de convivencia entonces seamos claras y digamos las cosas claras yo simplemente lo matizo para que no haya

ha sido un sistema ejemplar pero yo creo que tiene que revisar un poquito porque ya no lo es más

por las cosas que se han oído en el uso de la palabra de quienes me han precedido pareciera que estamos hablando de las tablas de moisés nuestro trabajo en este parlamento y modificar leyes si queremos y hay voluntad de mejorar ensanchar y ampliar el derecho tenemos posibilidad y capacidad de hacerlo incluso tenemos el mandato de hacerlo no estamos hablando insisto de las tablas de moisés gorospe andrea desioa konpartitzen dugu

porque en lo que me quede aquí tengo muy claro que me voy a dejar la piel por rearmar el bosque porque también tengo claro que espinas ya hay se vean o no se vean nuestro discurso tiene esa intención firme de proteger y de repoblar pero andando en cualquiera de los casos todo el respeto
todo el cariño y todo lo mejor por parte no solo mía sino del conjunto de elkarrekin podemos en esta nueva etapa besterik ez mila esker eskerrik asko

moción desde elkarrekin podemos queremos volver a poner en el centro del debate parlamentario los cuidados una tarea históricamente invisibilizada y fuera

políticas tareas que han recaído y continúan recayendo sobre los hombros de las mujeres

ponemos sobre la mesa soluciones para la atención de las personas en situación de dependencia

de tres informes recientes de tres procedencias bien distintas pero que reafirman lo que muchas vecinas y vecinos en euskadi ya saben porque lo están viviendo en carne propia muestran que tenemos listas de espera para atender a las personas mayores y dependientes en euskadi que necesitarían tres años para

el limbo de la dependencia es decir se les ha valorado pero no se les da acceso a ningún servicio o prestación y a esto hay que sumar la larga lista

o en gipuzkoa las huelgas del servicio de ayuda a domicilio la situación injustificable y anacrónica de las trabajadoras de hogar los problemas indiscutibles del sistema

altamente feminizado y que presentan numerosos problemas que no se terminan de afrontar no son hechos aislados son la expresión de una crisis que no parece quererse ver demasiado con este panorama se puede afirmar sin titubeo que hay una mala

una mala gestión de los conflictos laborales y no hay directamente gestión de la crisis de los cuidados que estalla en las vidas cotidianas

mujeres y de muchas familias los cuidados la atención a las personas mayores a la infancia y a la adolescencia a las personas vulnerables la igualdad la justicia social evidentemente prioridades de este gobierno los cuidados han estado sumergidos en las profundidades de un sistema que de continuar así pone en riesgo las vidas la reproducción social y desde luego la sostenibilidad de todas elkarrekin podemos propone con esta moción parar y pensar sacar el debate a la superficie con el firme propósito de que esos cuidados formen parte de la centralidad de la denominada vasca y creemos que es indispensable abordar esta agenda la de la gente siempre desde una visión

una visión feminista y trasformadora porque la simple distribución de tareas es importante pero no suficiente si solo se limita

pero por sí solo no va a solucionar la crisis de los cuidados los cuidados son un tema que abarcan tantas dimensiones que es un tema tan amplio que resulta complejo de abordar

proponemos también centrar el debate y la búsqueda de soluciones desde la mirada al conjunto del sistema de servicios sociales pero centrándolo en la atención a la dependencia y en el impacto que las políticas de atención a la dependencia tienen en la vida cotidiana de la gente pretendemos hacerlo con una mirada a lo concreto en primer lugar a las personas que son dependientes y en segundo lugar a las competencias que tiene este gobierno para solucionar

del sistema y a las que podrían serlo pero no lo son creemos que este debate debe darse necesariamente teniendo como marco y horizonte algunas cuestiones

desigualdades creemos que la primera de esas cuestiones es la de que los cuidados se constituyan de verdad en un derecho y los poderes públicos asuman de verdad la responsabilidad de garantizarlo apostamos por un sistema público y universal hay que acabar con las desigualdades e injusticias que sufren las personas en función

de residencia para acceder a los cuidados necesarios para una vida digna hay que sacar los cuidados del ámbito de lo privado

de los poderes públicos de las empresas privadas y de la sociedad en su conjunto para avanzar hacia una organización social y económica que ponga en el centro las vidas

tienen que dejar de ser sí o sí una responsabilidad única de la familia

tercero es la igualdad entre mujeres y hombres porque los hombres también deben integrar los cuidados en todas las actividades de su vida y no solo en sus casas sino también en la actividad política los hombres tienen que incorporar este tema en el centro de las agendas de relegar los temas centrales que hacen que las vidas de las personas se queden en un segundo plano

hay que politizar los cuidados y es imprescindible buscar para eso soluciones estructurales

porque también y por si no se han dado cuenta

y es que las mujeres tenemos derecho a elegir si cuidar o no cuidar

o por la presión social o institucional

queremos avanzar hacia un horizonte en el que el sector laboral de los cuidados tenga por fin el reconocimiento social y material que le corresponde trabajadoras de hogar trabajadoras sociales trabajadoras de residencias y de servicios de ayuda a domicilio llevan años luchando por la calidad de los servicios porque la dignidad de sus condiciones laborales impacta directamente en la calidad de los servicios

de que el gobierno vasco afronte esta situación con altura de miras y una visión estratégica de futuro no queriendo pasar de perfil como hasta ahora que ni siquiera

con estos cuatro objetivos en el horizonte proponemos con esta moción una necesaria revisión y mejora de las políticas de atención a las personas dependientes

hain zuzen ere para intentar resolver esas necesidades de cuidados en situación de dependencia se creó el sistema de atención a la dependencia que en el caso de euskadi se encarga en el marco del sistema de servicios sociales que como mencionaba antes tiene problemas estructurales que no se terminan de afrontar y de los que parece que tampoco se quiere oír hablar aunque insistamos problemas que impactan especialmente en el los servicios sociales municipales que son la puerta de entrada al sistema los servicios más próximos a la ciudadanía

están haciendo de muro de contención a todo el sistema son las que tienen que inventar

en el municipio de bilbao a más de setecientos casos por profesional

sino que imposibilita cualquier proceso mínimamente individualizado

es el mandato que la ley de servicios sociales impone a nuestros servicios sociales municipales ustedes me podrán decir y me van a decir seguro que no podemos estar hablando de esto aquí porque esto es competencia municipal

es competencia de este gobierno y que no se escondan detrás de esas competencias para lavarse las manos porque el gobierno es el responsable del conjunto del sistema y no es aislado no es un problema de un ayuntamiento que se organice mal es el producto de un sistema que hace una mala e insuficientemente apuesta estratégica

tenemos por ejemplo desde el año dos mil dieciséis el informe del ararteko que da muchísimas y muy buenas pistas sobre cómo resolver los problemas del sistema de servicios sociales

y mala gana tres años y no hemos visto ni un solo gesto por hacer un buen uso de ese informe y no es nuestro

oparotasunean ere también había un grupo amplio de recomendaciones para desarrollar programas y servicios sociales municipales de los que tampoco oímos ni hablar según el observatorio estatal de la dependencia para el año dos mil dieciocho en euskadi el equilibrio

muy por encima del treinta y ocho por ciento de la media del estado y obviando la recomendación de la propia ley que dice que la prestación económica es una excepcionalidad

que sepan que están detrás de comunidades como andalucía y galicia también imaginamos que nos dirán

atañe a las competencias forales y tampoco debemos o podemos meternos pero repetiría lo que he dicho hace un momento respecto de los municipios hay responsabilidad y hay posibilidad lo que no tengo tan claro es que haya voluntad tenemos tres territorios históricos con tres modelos de atención diferentes y eso

u otros derechos por ejemplo si vives en errenteria tardarán seis meses en que te den una cita de valoración si vives en portugalete un mes y medio para que

si es que no te invitan a aceptar la ayuda económica para borrarte de la lista de espera cuestión que plantean como incompatible pero no es tal

y esto en qué se traduce insisto en que no hay igualdad para las personas según donde vivan

siendo así con esta iniciativa desde la honestidad traemos medidas concretas y posibles todas en el marco de las competencias planteamos que se reconozca que hay una necesidad urgente de mejora de la atención que pongamos sobre la mesa

el rol de liderazgo que le corresponde por ley y que en colaboración con las diputaciones y ayuntamientos en el marco de los organismos existentes

con el caos de la dependencia para ello instamos a que se ejecute el plan de los servicios sociales un mandato y un compromiso adquirido en el que ya van tarde y mal instamos a solucionar las desigualdades de los tres territorios otro mandato adquirido a través de la aprobación de la ley de servicios sociales que también están incumpliendo además instamos al gobierno a que en colaboración con las diputaciones forales ayuntamientos y con la participación de otros

en tres meses realice un diagnóstico de atención a las personas dependientes

es un dato pero también es falta de transparencia y es ocultar la realidad para pintarnos un oasis que no es tal

que ya están incumpliendo ustedes otra vez planteamos que se cumpla lo que regula la ficha social que tampoco se está cumpliendo

que tampoco lo están cumpliendo planteamos mejorar en definitiva el sistema en su conjunto con la interoperabilidad de datos compromiso está cumplido mediante un acuerdo en esta cámara y que tampoco están ustedes haciendo ningún caso nos dejamos cosas importantes para llegar a un acuerdo cosas que nos dejamos porque entendemos que los acuerdos son importantes y consideramos que a pesar de haber renunciado

a la creación de un plan de choque en el ámbito de la dependencia para no dejar en el tintero todos esos empleos y toda esa riqueza que se está perdiendo por apostar por las ayudas económicas

consideramos que no pasa nada por dejar esto y consideramos honesta y sinceramente que nuestra propuesta se ha visto enriquecida

de los grupos veremos e invitamos desde luego a todas a votar favorablemente a nuestra propuesta lo que sí tenemos claro es que es una proposición sencilla que no pide grandes cosas más allá del cumplimiento de lo que ya está comprometido

erdigunean jarri nahi dugu porque no hacerlo sería seguir metiendo la cabeza debajo del ala y estoy segura de que eso no es lo que queremos ninguna para ninguna de las personas dependientes que hay en euskadi

no voy a poner en duda esos aspectos en los que aparecemos marcando diferencia ni esas diferencias porque además me parece que nos lo hemos currado

a mí lo que me genera duda es que esos mismos informes que se utilizan para hacer referencia a esas distancias que son los que utilizó la señora artolazabal bueno no voy a entrar mucho en eso pero también refieren otros datos

y que ella pues omitió por ejemplo hace referencia

y usted nos hablaba de que la gente quería quedarse en casa pero precisamente en estos servicios

como la ayuda a domicilio y fíjese usted por donde la teleasistencia que por cierto es responsabilidad suya responsabilidad directa y también

y que hay un desequilibrio entre el gasto y la cobertura que sugiere un cierto problema de eficiencia

me parece que si la atención a la dependencia constituye como dijo la consejera artolazabal un reto para euskadi y por ello las políticas de este gobierno se basan en el envejecimiento activo en la inclusión en la buena gobernanza y la plena participación y el máximo confort para las personas dependientes considero que el margen de mejora

y más teniendo en cuenta el liderazgo que hemos tenido como comunidad en todas estas políticas y el marco que nosotras mismas nos hemos dado ese marco del que nos hemos dotado

y de su desarrollo y creo que en este punto diez años después de la aprobación de la ley de servicios sociales y camino al tercero desde la aprobación de la cartera de servicios sociales

ya exigir al gobierno otro tipo de respuestas más allá de ver qué dicen los informes de cómo estamos como responsable sobre todo

en la moción hay elementos que son claves para lo que es la atención a la dependencia como es el eje uno

o el eje cinco de la cooperación entre sistemas ya que la atención a la dependencia debe ser socio sanitaria por lo que los avances

son fundamentales pero no sabemos en qué está ese plan estratégico porque tampoco se ha realizado la evaluación intermedia que estaba prevista para el primer semestre del dos mil diecisiete

y que ahora en una respuesta parlamentaria nos decía la señora artolazabal que estaban viendo cómo se iba a hacer

la señora guanche y no voy a incidir en él pero habla de las diferencias que hay entre territorios

y mencionó gipuzkoa la sailburu aipatu zuen gipuzkoa

y tampoco vemos grandes avances en lo que es la implementación del procedimiento básico de atención

tener mucha información sobre lo que está pasando en la dependencia que lo mencionaba también la señora sánchez en la interpelación esa ausencia de datos sobre las necesidades reales que tienen las personas y ahí también tenemos otro decreto del dos mil quince con muchas dificultades y bueno ikusten dugu nola bakoitzaren

del plan de atención socio sanitario eta yo me acordé de cómo el lehendakari hablaba de un plan nórdico para la atención al envejecimiento y pensé

también es verdad que el plan de atención socio sanitario la cartera de esos servicios socio sanitarios está siendo muy limitada y en la medida que los decretos y los servicios

no se impulsen y no se desarrollen es difícil que haya una cartera socio sanitaria con lo cual yo entiendo que es una situación bastante complicada porque tenemos un marco

circular en una variante muy positiva y lo estamos paralizando lo estamos paralizando y además nos quedamos en esa autocomplacencia de bueno de decir mira en las comparaciones con los demás salimos muy airosos es que nosotros nos hemos puesto a nosotras mismas

y eso es lo que nos hace referentes no los resultados sino esos compromisos que adquirimos esa es la importancia guk zaintzak erdigunean jartzea ahalbidetuko duen zerbitzu publikoen

amaitzen joan no vale siempre estar buscando escusas no vale no vale no vale escurrir el bulto

hay que ponerse a ello y aprovechar que tenemos un marco de amplios consensos un marco que nos sitúa en una situación privilegiada y hay que mantener esa situación de excelencia

prioritaria para todas las instituciones involucradas que son varias y para el papel también que le corresponde o que le correspondía asumir al gobierno vasco un papel muy claro

la función de tutela la función de ser legislador

al sistema vasco de servicios sociales como decía la ley de servicios sociales es del año dos mil ocho y con ocasión de su décimo aniversario tuvimos

de hablar sobre esta cuestión en una mesa

grupos políticos y tenemos que decir que las conclusiones de dicho foro

dejaron mucho que desear y que se puso de manifiesto

cierta incapacidad del gobierno en haber asumido el rol que le correspondía en todo el sistema vasco de servicios sociales configurado como tal en la ley aprobada en el dos mil ocho

de las intervenciones sobre este asunto que no era fácil el tema no era fácil abordar

llegar hasta los objetivos previstos sobre todo teniendo en cuenta que el punto de partida tampoco era el mismo entre las instituciones

algunas instituciones específicamente tenía que hacer un mayor

en lo que respecta al gobierno vasco nosotros también hemos puesto de manifiesto y además creo que también eso se ha plasmado en iniciativas concretas en esta cámara pues cierta inacción del gobierno vasco en el retraso de la aprobación de la normativa correspondiente voy a citar un ejemplo que también ha sido señalado aquí y que también se recoge en la enmienda de transacción

el decreto correspondiente pues es un mandato del parlamento del año dos mil diecisiete por unanimidad y recientemente tuvimos también que debatir sobre esta cuestión porque la actualización de los decretos correspondientes a este asunto no estaban todavía

hablemos del espacio socio sanitario hablamos de atención a las personas crónicas

la asistencia domiciliaria que como se ha dicho aquí hay un amplio margen de mejora hablamos de la teleasistencia en definitiva yo creo que sí podemos concluir

y de ambición de este gobierno a la hora de abordar las competencias que tenía en esta materia de servicios sociales que sí que es cierto que también muchas de ellas son compartidas y otras ejercidas por otras instituciones

en el ámbito de la comunidad autónoma vasca en euskadi como son las instituciones

y por otra parte como ya lo hemos puesto también de manifiesto en reiteradas ocasiones que hemos hablado sobre este tema es el tema de la financiación

pidiendo a instituciones concretas como son las diputaciones y ayuntamientos que presten más servicios y den más prestaciones en el marco de la cartera de servicios aprobada y que se atiendan a las listas que espera

territorios pues es ineludible hablar de la financiación

más pronto que tarde se va a tener que tocar y nosotros también aquí no entendemos la posición de algunos grupos que no quieren abordar esta cuestión de forma abierta de

a aquellas instituciones que tienen competencias específicas en la prestación de servicios en este ámbito que tengan los recursos suficientes para hacerlas frente y me estoy refiriendo a la diputación a las diputaciones y a los ayuntamientos por lo tanto no se puede demorar el abordar

sobre el reparto de los recursos dentro de euskadi entre las diferentes

fijados en la propia ley de aportaciones por lo tanto nosotros no hemos entrado a suscribir la enmienda de transacción pero obviamente no la vamos a obstaculizar compartimos

tratado de influir y que algunas cuestiones concretas fueran abordadas a nuestro juicio con un poco más de precisión y de realismo llendo realmente al grano yo

de orejas al gobierno y que obviamente las evaluaciones que están pendientes en relación al plan estratégico de servicios sociales que se traigan de una vez por todas a esta cámara por otra parte

desigualdades que existen entre los territorios históricos

que se haga un informe diagnóstico sobre la atención a las personas dependientes en este momento en colaboración con las diputaciones y los ayuntamientos también pedimos que se remita a la cámara de una vez por todas y esperemos que sea la definitiva los decretos pendientes

con el desarrollo del plan de atención sociosanitaria con un cronograma de acciones y presupuesto a cumplir

y creo que también es interesante la introducción del tema de la mejora de la interoperabilidad de los datos en definitiva creo que esta iniciativa o el acuerdo alcanzado permite avanzar y sobre todo no tenía que ser nuevamente así pero parece ser que es necesario volver a poner deberes al gobierno y esperemos

iniciativa y que no tengamos que tener enseguida un debate sobre estas cuestiones o con otras cuestiones colaterales que tienen que ver como la dependencia con las personas mayores porque el gobierno vasco

en perjuicio de los ciudadanos vascos no haya cumplido los compromisos que también adquirió en su momento en el programa de gobierno

vasco de servicios sociales en la intervención del grupo proponente en la moción que precede

se presentaba por el propio grupo proponente una situación en la dependencia dentro de nuestra comunidad autónoma

un poco catastrofista y se acusaba al gobierno de una mala gestión y hoy también pero no hace referencia a datos recogidos en los últimos dictámenes del observatorio de la asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales

realiza sus estudios con carácter anual dentro de dichos informes se señala

generando cuarenta y seis empleos por millón bastante superior a la media nacional establecida en un treinta y siete coma siete por ciento el gobierno vasco

más de cuatrocientos cincuenta y seis millónes de euros es decir el ochenta y cinco por ciento del gasto público la administración general del estado setenta y cuatro millónes de euros es decir un catorce por ciento del gasto público

fue recortado en todas las comunidades de régimen común mientras que en el país vasco y navarra se mantuvo el equivalente a ese nivel gracias a su modelo de financiación por lo que

el quebranto que el resto de comunidades autónomas y eso a pesar de la reforma por el partido popular en el año dos mil doce fecha en la que el estado dejó de asumir su compromiso de financiación en el nivel mínimo desapareciendo el nivel concertado según el último informe del observatorio de la dependencia publicado el pasado

millónes de euros la supresión de una de las fuentes de financiación del sistema nivel acordado la reducción de los recursos que se destinan

y la supresión de las cotizaciones a las cuidadoras de familiares que afrontaba la seguridad social son las razones que han llevado a españa a este escenario por cierto las cotizaciones a las cuidadoras las acaba de recuperar el gobierno de españa de pedro sánchez recientemente dentro de ese informe del observatorio solo aprueban cinco comunidades teniendo la mejor calificación castilla león andalucía país vasco castilla la mancha y madrid el resto

por dependiente atendido en el país vasco es de un trece por ciento superior a la media nacional

a la media nacional en un cincuenta coma seis por ciento y estando su tasa de cobertura en ocho coma dieciséis puntos por encima de la media nacional contamos con un plan estratégico sociosanitario dos mil diecisiete dos mil veinte donde se pone de manifiesto la importancia de la coordinación entre ambas y en eso

contamos en euskadi con una puntuación en la atención a la dependencia

siendo la única comunidad autónoma que lo consigue por tanto no podemos presentar una situación catastrofista porque se aleja de la realidad existente

demagogia con estas cosas sin embargo eso no quita para que podamos seguir dando pasos para mejorar nuestro sistema de dependencia y en eso yo creo que todos

en la equiparación de la atención entre los tres territorios históricos pero hay que reconocer dónde estamos la atención a la dependencia es una cuestión

vulnerables atendiendo sus necesidades de cuidados aseguran desde el observatorio que el sistema de dependencia tiene una gran capacidad de generar

de empleo muy feminizado y debiendo de crearse además puestos de trabajo de calidad y no es una política de gasto social sino una inversión social puesto que según los datos del último informe publicado

de cada cien euros del gasto público en dependencia las arcas públicas recuperan

es importante ofrecer los mejores recursos de calidad y respondiendo a lo que prefieran los dependientes atención en sus domicilios en residencias etcétera

la atención a la dependencia en nuestra comunidad autónoma es buena

lo que evidencia el compromiso de las instituciones vascas con la dependencia no estamos de acuerdo con la iniciativa planteada

pretende dar una imagen catastrofista y donde hemos visto también una diferencia

iniciativa y lo que al final sale plasmado en la enmienda transaccional y en el discurso

hoy aquí por eso vamos a defender la enmienda a la totalidad presentado por el grupo nacionalista vasco y el grupo socialista donde se señala el parlamento vasco inste al gobierno vasco a que siga trabajando

en colaboración con el resto de instituciones vascas y entidades del tercer sector en el marco del consejo vasco de servicios sociales y el órgano interinstitucional

vasco de servicios sociales por otro lado también se insta al gobierno vasco que en el marco del desarrollo del plan estratégico de servicios sociales realice las acciones de seguimiento y previstas en el apartado cinco del plan

seguimiento y evaluación y actualización del plan porque ya están previstas dentro

y por último se insta a las instituciones vascas a mejorar en la interoperabilidad de los datos para poder así realizar operaciones estadísticas que sirvan para

en torno a la mejora del sistema porque creemos que eso también es importante podríamos estar de acuerdo con puntos

transaccional de hecho los puntos uno y seis coincidían con los recogidos dentro de nuestra iniciativa obviamente también tenemos que estar de acuerdo con el cumplimiento de una iniciativa anterior aprobada en este parlamento como no podía ser menos obviamente pero creemos también que existen ya mecanismos de evaluación que evidentemente pueden ser utilizados para conseguirlo y por eso nosotros vamos a apoyar nuestra enmienda

ez da berria mientras que en otros lugares del estado e incluso a nivel internacional se pone el sistema vasco de servicios sociales como ejemplo a seguir la iniciativa

y con coberturas infinitamente más altas que la del resto del sistemas estatales

incluso en las gobernadas por podemos aquí se vierten todo tipo de críticas al sistema muchas de ellas partiendo de premisas y datos erróneos a nuestro juicio mezclando normativas estatal y autonómica

informes de distintas épocas calidad de servicio con las condiciones laborales de las personas prestatarias de los mismos un poco de todo recoge la moción y por utilizar las misma expresión que las proponente un caos

aprovechamos para negar la mayor el sistema no es un caos como usted dice señora guanche tanto en la moción como en el día de la interpelación y hoy también lo ha mencionado

como le he dicho incluso representantes de su propio partido han acudido a euskadi para aprender del sistema a fin de poderlo implementar en aquellos lugares donde tienen responsabilidades de gobierno pero no solo lo décimos nosotras las representantes de los partidos que sostiene al gobierno vasco y la señora kortajarena también lo ha reconocido

considera que euskadi destaca en este ámbito obteniendo la excelencia se ha dicho también afirmando que la cobertura de la dependencia es del siete coma setenta y cinco en euskadi nivel muy superior a la media del estado cinco coma ocho por ciento que no es suficiente que hay que seguir mejorando estamos de acuerdo

muchas veces hemos comentado que la mejora ha de ser continua realista sin caer en la autocomplacencia pero reconociendo y poniendo en valor el sistema potente

porque con críticas tan exacerbadas el sistema es un caos es difícil alcanzar acuerdos para avanzar en la mejora porque son además de injustas y exageradas inciertas

en cuanto al punto tercero de la iniciativa original que pretende solucionar las desigualdades en la atención a la dependencia de los territorios históricos obvian

la aprobación del decreto de cartera y su entrada en vigor que precisamente busca que las diferencias en las prestaciones en araba bizkaia y gipuzkoa sean mínimas usted

en un sistema en el que todas las personas de la comunidad autónoma tengan los mismos derechos independientemente del territorio en el que vivan

por ley respecto al punto cuarto referente a la realización de un informe diagnóstico sobre la atención a las personas dependientes no vemos

la información que se pretende recopilar es pública en euskadi las diputaciones forales instituciones competentes en dependencia remiten todos los datos cifras el sistema de información sobre la dependencia del ministerio por lo tanto no tiene sentido a nuestro juicio hacer un trabajo que ya se viene realizando ser responsables con los recursos públicos también hemos de ser responsables con las competencias de cada nivel institucional siendo la dependencia competencia de las diputaciones forales en todo caso a ellas correspondería realizar la encuesta de satisfacción de los y las usuarias si así

o si así se solicitaran en las juntas generales de los distintos territorios históricos en cuanto al plan de choque del empleo en el sector de la

de la transacción pero es cierto que usted ha hecho mención al mismo en su discurso por lo tanto yo también le voy a contestar como usted conoce bien el gobierno

kortajarena ha mencionado mediante la colaboración estrecha

se convoca un dispositivo formativo anual del que un altísimo porcentaje de la demanda total se centra en la formación vinculada a la dependencia beraz

eskerrik asko mahaiburu andrea a ver si no me pierdo que he tomado nota

no quito reconocimiento a lo que se hace bien no lo hice en la interpelación y no

el caos de la dependencia es el nombre que le han puesto en uno de los documentos no es que yo diga que el sistema de servicios sociales es un caos es que llaman a la situación que se produce en el conjunto del estado en

lo llaman el caos de la dependencia y sí he utilizado esa expresión tal vez nos hemos entendido mal

lo que sí quiero es diagnosticar para ser mejor porque creo que no querer hablar de las cosas que no se hacen bien o por lo menos no querer hacerlo en los foros públicos

nos limita nos limita y sinceramente yo tengo como una sensación de frustración porque

estamos constantemente reconociendo que existe un problema en el marco del sistema vasco de servicios sociales hoy con la dependencia con la infancia en otros momentos con otras tantas cosas de las que hemos hablado

no terminamos de conseguir avanzar de hacer más y no es una frustración tanto política como

porque sé que hay unas instituciones que me van a cuidar y yo a día de hoy tengo miedo a hacerme mayor porque no sé si hay unas instituciones que me van a cuidar y como vengo

a soportar sí señora sánchez no soy catastrofista hago una de la labores que me corresponde se lo dije el otro día se lo repito hoy

en un parlamento que es la labor de impulso esa labor de impulso podemos coincidir o no coincidir en el diagnóstico que hacemos en los elementos que hacemos pero lo que usted no me puede decir es que yo soy catastrofista por venir aquí a señalar cosas que no se están haciendo bien y que el propio gobierno reconoce que no se están haciendo bien dicho esto igual

pero es que el texto de los informes dice claramente efectivamente euskadi es uno de los lugares donde más se invierte

porque lo que también dice es que se gasta mucho pero no se gasta bien entonces habrá que hacer una análisis sobre si la inversión que se está haciendo es adecuada o no el informe que usted ha señalado efectivamente

preeminencia de la valoración que se hace del sistema de servicios sociales en euskadi

de lo que le mantiene ahí arriba tiene que ver con esa inversión que se está cuestionando si es eficiente o no entonces digo yo tan malo es proponer parar reflexionar revisar y plantear otra forma de hacer porque ojo

elementos que son compromiso de este gobierno porque es lo que dicen las leyes los planes y todos esos cambios de paradigmas tan bonitos que viene siempre la señora artolazabal a presentarnos vale dicho esto vamos por

argumentos distintos a los de la moción claro que he utilizado porque no me suele gustar yo sé que no siempre no escuchamos todas a todos pero no me suele gustar venir a la cámara a repetir

lo que sí considero es que la apuesta política que se hace en concreto desde el departamento de empleo y políticas sociales

y considero que no hay un interés real en ejercer el liderazgo que le otorga la ley y eso lo considero y no tengo ningún tipo de rubor en mantenerlo en ningún foro si apostamos de verdad por el sistema de servicios sociales hablemos sobre cómo mejorarlo a lo largo de todo el tiempo que llevamos de legislatura se han traído un montón de iniciativa entorno al sistema y casi ninguna sale

usted y sé que su voluntad es real yo lo que quiero que quede constancia en esta cámara es que nuestra iniciativa de hoy que además va a ser apoyada por los otros grupos nace posibilidad y de la capacidad de querer hacer las cosas mejor porque de verdad que podemos hacer las cosas mejor seguiremos desde luego trabajando

adibidez esatea zuen zuzenketan que el gobierno continúe haciendo la evaluación

que tenemos los mismos derechos reconocidos por ley pero no se ejecutan no se pueden ejecutar de la misma manera

hay unos datos yo he traído unos porque tenía a mano pero por ejemplo desequilibrios y

interterritoriales en lo que son los centros de día para mayores

desequilibrios y desigualdades en lo que son los centros residenciales para personas mayores y hay importantes trescientos cuarenta y ocho gipuzkoa doscientos setenta y tres

en araba desequilibrios y desigualdades en lo referente a la prestación económica para cuidados importante porque

con lo cual los mismos derechos reconocidos pero no la misma posibilidad el mismo derecho de ejecutar

señora guanche usted en su primera intervención señalaba

que se mejoraran una serie de cosas que se traiga el decreto de centros residenciales cuanto antes y

me venía a la cabeza la comisión de empleo y políticas sociales del pasado martes

ustedes apoyaban una iniciativa del grupo eh bildu para volver a rehacer el informe de impacto de género del decreto de centros residenciales porque no les gustaba el informe de impacto de género que existía y

en el punto anterior en el punto tres estábamos diciendo que una de las razones por las que no

de ley de la reforma de la renta de garantía de ingresos era porque no contaba con todos esos informes

tampoco le gusta el informe de impacto de género y quieren que también vuelvan a hacer ese informe y que vuelvan a rehacer el decreto pero también hoy pide que ese decreto venga cuanto antes y que lo tengamos cuanto antes hombre

desde luego es un poco incongruente y yo recuerdo por otro lado que tenemos una ley como es la ley de vivienda que

no contaba con todos esos informes y es una magnífica ley con lo cual no es el único ejemplo que ha venido a esta cámara

y se permitió debatir sobre la misma yo lo que veo es que muchas veces

son palos en las ruedas o dirigidas al proceso electoral en el que nos encontramos

que todos en la gran mayoría de las intervenciones hemos puesto de manifiesto que es un buen sistema el que tenemos evidentemente todos los sistemas son mejorables

el marco es bueno y hay que seguir haciendo esfuerzos para avanzar yo creo que en eso estamos de acuerdo pero sin olvidar en ningún caso dónde estamos y

yo he expuesto en mi primera intervención las argumentaciones por las cuales nosotros no apoyamos la enmienda transaccional de hoy y sí vamos a apoyar
la enmienda transaccional firmado por el grupo nacionalista vasco y el grupo socialista nada más eskerrik asko

baina hau esanda no tenemos miedo a debatir de nada

que lo que tenemos que hacer es cumplirlos y es verdad que en algunas de las cosas

la evaluación del plan estratégico y lo tenemos que reconocer siempre que nos tachan de autocomplacencia es cierto que se anda tarde y que también es verdad que es difícil porque se ven involucradas diferentes instituciones pero ya sabemos cuál es la arquitectura institucional que tenemos en este país y dicho esto entendemos que habiendo los instrumentos que existen ya en la propia ley no entendemos que sea necesario un nuevo plan porque podríamos vernos otra vez realizando un plan que no se va a cumplir entonces creemos que es más eficaz y más importante utilizar

y hacerlos cumplir y es que es lo que ya la propia ley de servicios sociales tanto en el artículo veinticuatro habla de cómo se tiene que hacer también el artículo treinta y cinco

el tema de impacto de género etcétera quiero decir que no porque se ponga punto por punto en ese plan estratégico que cree que va a solucionar todo el atasco o lo que sea

y además se reconocía y sigamos avanzando pero intentando también que las críticas sean de forma constructiva y en forma de avanzar para no quedarnos siempre solo con el trazo grueso e intentar

avanzando porque creo que el sistema es bueno y que evidentemente tiene mejoras y que hay cosas que hay que rectificar y me quedo con eso en el que

el sistema mejorarlo en lo posible pero no creo que la aprobación de nuevos instrumentos vengan a solucionar

hablaba la proponente ni mucho menos creo que el intentar incluir nuevos planes no soluciona porque el papel lo admite todo lo he dicho muchas veces hay que hacer que sean lo que tenemos en vigor y que puede permitir avanzar

de forma lo antes posible y de la forma más coordinada posible para que continúe avanzando el sistema besterik ez mila esker eskerrik asko

ahuleziak edo gabeziak konpontzeko como decía el objetivo de esta iniciativa es paliar el déficit de atención de los niños y adolescentes

especialmente en los territorios de álava y de gipuzkoa porque sorpresivamente nos encontramos que esta realidad sí está siendo atendida

este grupo y esta parlamentaria en concreto tuvo conocimiento de esta noticia a raíz de ciertas informaciones que aparecieron en varios medios de comunicación y

a la que obviamente quiero agradecer toda la información proporcionada y también las

que se dieron aquí que nos dieron aquí en la comisión hace dos días en la comisión de salud sobre la problemática

en el ámbito escolar hablaban especialmente de la problemática

comidas de las dosis de insulina relacionadas con las comidas del control de la ingesta posterior

en cantidad y permitir sobre todo una posible hipoglucemia y todo esto

variables como la práctica deportiva que haya hecho el niño o la niña

en definitiva pues también esas cuestiones inciden en

de todo ese proceso en definitiva son niños que por tanto requieren una atención absolutamente

tiene unas especifidades propias no tiene nada que ver con los hábitos de vida es una enfermedad autoinmune crónica exige un seguimiento exhaustivo preciso

y no existe una dosis concreta a administrar en cada momento por lo tanto estamos hablando de que estos niños en el ámbito escolar tienen unas necesidades presentan unas necesidades

cubiertas por no hablar también del impacto

una situación de estas características el impacto familiar la desatención de los niños en el colegio así hay que decir que lo sufren las familias

este momento tan sensible de la comida que muchos niños se ven obligados a cambiar de colegio

reducir sus vacaciones incluso abandonar el trabajo estamos hablando según los datos del gobierno vasco aunque creemos que hay más casos pero los datos que nos ha proporcionado el gobierno vasco en sucesivas respuestas parlamentarias son ciento seis niños a lo largo de toda la geografía de euskadi

estudiar este asunto nos hemos encontrado con que la regulación es un tanto también obsoleta es necesaria su revisión hablamos de un protocolo del año dos mil dieciséis donde se dice que la atención recae

sí se prevé la adopción de medidas excepcionales pero esta cuestión especifica no se ha cumplido nosotros precisamente una de las cuestiones que queremos cambiar

es la voluntariedad del profesorado en la atención a estos niños es necesaria una adecuada formación en el personal que atiende a estos niños con diabetes

tenemos que decir que la instrucción de los jantokis de los comedores escolares

deniega esa atención individualizada que precisan estos niños habla de una dieta diabética que solo como todos sabemos y por las

hemos recogido las peticiones de la asociación y planteamos una proposición no de ley pero yo también quiero hacer referencia al amplio acuerdo suscrito por todos los grupos a los que vuelvo

realizados especialmente a los grupos que apoyan al gobierno y especialmente también a los

pedimos específicamente por lo tanto modificar dicha circular y pedimos también garantizar en todas las etapas educativas esa atención individualizada el acceso normalizado al comedor en condiciones con el resto del alumnado y también que se garantice a lo largo de todo el horario escolar una atención adecuada hablamos para ello

humanos que son adecuados que estén debidamente formados para la administración de la insulina y supervisión de la ingesta por diabetes tipo primero antes de la comida o también en otros momentos en los que pueda ser

niños tengan el acompañamiento debido otra de las cuestiones que también se nos reclamaba era ajustar de forma individualizada el menú ordinario a la pauta medica de raciones de hidratos de carbono para cada niño niña y por otra parte también

se van haciendo mayores y a esos niños también hay que enseñarles a ser autónomos y también a gestionar su propia enfermedad y por eso también hemos pedido que se desarrollen planes personalizados para cada niño y niña y que vaya aprendiendo obviamente un niño pequeño pues no puede tomar decisiones

las múltiples circunstancias que rodean

a esta patología pero que en la medida de lo posible pues ese niño según se vaya haciendo mayor también

su propia enfermedad señorías sí que consideramos desde el grupo popular que al parte del margen de mejora de atención

en estos niños sí me gustaría detenerme en varios aspectos creo que esta iniciativa con las medidas que se plantean hace que el trato y la atención a estos niños sea más justa y sobre todo que sea la atención necesaria y la atención que necesitan estos

porque hemos conocido teníamos conocimiento ya por el testimonio de la asociación de que estos niños o niños que en semejantes circunstancias estaban siendo

por la voluntariedad de un equipo de enfermeras que se trasladaba de los centros de salud a los colegios

entendemos que si hablamos además de equidad un principio que preside la salud de forma muy clara

los niños en bizkaia estaban siendo atendidos y los niños

y por otra parte también tenemos que decir que ya hay una experiencia en la comunidad de madrid una experiencia que esta puesta en marcha desde hace tiempo en donde se da atención no solo a estos niños sino al resto de niños que presentan

con la figura de la enfermera escolar que se traslada a los centros escolares cuando es preciso

solicitamos ese tratamiento igualitario en los comedores escolares de todos los colegios vascos y cubrir el déficit de atención que actualmente

para ello planteamos aparte de como decía modificar la circular del año dos mil seis elaborar un protocolo entre los departamentos de educación y salud

que se asignen como decíamos los recursos humanos necesarios debidamente formadas esa atención personalizada e incidir también en la coordinación por lo tanto creemos que con todas estas medidas bueno paliamos o mejor dicho

que actualmente existen en la atención a estos niños en los territorios

especialmente del partido nacionalista vasco partido socialista de las consejeras de y que dirigen los departamentos de educación y salud y solo desear que

necesidad que necesita de urgente respuesta

lo antes posible y que por lo tanto pues por las familias puedan estar satisfechas y estén tranquilas

a sus niños en los colegios en los jantokis están debidamente atendidos besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos

lehendakari consejera y consejeras compañeros y compañeras

este y otros múltiples problemas que trabajamos en políticas de salud son susceptibles de consenso y de organizar un gran pacto en defensa de la sanidad pública vasca por todos los grupos parlamentarios de esta cámara

insisto ahora son políticas muy sensibles tenemos un buen sistema y organizarla profundizar la profundización en su calidad y en su democracia nos concierne a todos y a todas por eso

de que haya habido de nuevo consenso en este punto de políticas de salud que tiene que ver con una orientación comunitaria de nuestros servicios de atención primaria solamente tres reflexiones muy breves por la hora que es para no aburrir todo el mundo sabéis lo que es la diabetes aumento de azúcar en la sangre que se llama hiperglucemia y que

que se hace en las células beta del páncreas órgano que está de bajo y detrás del estómago

nuestro propio cuerpo agrede ataca deforma

por lo tanto es necesario un control permanente de la glucemia

o azúcar en sangre y un control permanente de la dosis

a introducir es un tema que se ha discutido a nivel internacional y hasta el nivel de autonomía y de autogestión en salud que es el objetivo

control de glucemia su propio control de introducción de insulina de forma permanente pues obviamente pasa un tiempo

pues hay un periodo en la vida del niño o de la niña que necesita ayuda ese periodo es el periodo en el ámbito escolar

no voy a repetir lo que la parlamentaria garrido la compañera laura ya ha planteado y plantearán otros y otros porque hemos estado discutiendo esto

también he tenido el placer de estar con mis compañeros y compañeras de bizkaia porque no pasa lo mismo

la primera algunas torpezas de algunos responsables de osakidetza producen este tipo de problemas

no puede contestar a una asociación de padres y madres de niños

que esto no entra dentro de la cartera de servicios de osakidetza es una contestación burocrática esto no es mi negociado

los pacientes diabéticos tipo primero niños o adolescentes que viven en vitoria

qué pensaba el director o quien fuese que ha contestado así a la asociación de padres y madres de estos niños que no iba a traer consecuencias este tipo de discusiones no entra en la cartera de servicios de osakidetza es un error

y ha ocasionado que nos entrevistemos con la asociación varias veces y ha ocasionado que la comisión de salud dedique

segunda reflexión hay algunos dirigente de osakidetza que piensan

en una consulta de calidad eficaz agradable en el hospital en este caso

consulta tratamiento pruebas diagnósticas complementarias punto

nosotros no somos personas en el hospital y en el centro distintas a cuando estamos en el parlamento

distintas a cuando estamos en tiempo de ocio somos la misma persona luego osakidetza necesariamente tiene que organizar la orientación comunitaria de esta atención

la responsabilidad de osakidetza y de sus profesionales no acaba en la consulta

y tercera reflexión si yo como parlamentario tengo que leer

extraordinario documento las líneas estratégicas del departamento de salud extraordinario documento el plan oncológico de euskadi buen documento

a plantear próximamente la señora consejera buen documento

por qué no lo leen también los dirigentes de osakidetza de las osi

quiere decir atención integral abordaje integral de la enfermedad políticas de promoción de salud políticas de prevención y así

y no perdemos el tiempo con estas tonterías todos y todas estamos de acuerdo con esta proposición no de ley

creemos muy conveniente una reorientación fundamental en clave comunitaria de las acciones de salud

y del departamento y una buena coordinación en políticas multisectoriales que tienen que ver con los niveles de salud de nuestra gente con nuestros niños y niñas diabéticas

porque sí son nuestra responsabilidad no ya de osakidetza sino de la administración pública en su conjunto

por el buen hacer de los inspectores de educación y por el buen hacer de la gente de atención primaria y de endocrino de cruces por qué no en álava

que ha considerado que la burocracia es el elemento central explicar a las asociaciones de afectados qué deben y qué no deben hacer no hombre no la burocracia no políticas de salud con las personas en el centro

autonomiaz eramateko después de la comparecencia

en la comisión de hace dos días y de la exposición de han hecho otros grupos entre ellos el grupo

los motivos que nos han llevado a debatir este tema en el pleno además creemos que la necesidad de poner en marcha las medidas que hemos acordado y firmado en la enmienda transaccional pues está más que justificada y si otra cuestión nos quedó

más que clara después de la comparecencia de es precisamente la contradicción que existe

entre esos datos y los que manejan las familias de los niños y niñas con diabetes hay bailes de cifras y de argumentos que la verdad es que no se entienden

sabemos con certeza cuantos niños y niñas enfermas de diabetes tipo

si ni siquiera sabemos cuántos de ellos y de ellas están escolarizados y en qué centros si no sabemos cuántas personas tenemos que atender de forma individualizada porque este tipo de enfermedad así lo requiere pues cómo vamos a saber con certeza qué medidas y qué recursos hay que poner sobre la mesa por eso lo importante antes de nada

los datos en cuanto a protocolos el departamento de educación nos remite a esa circular de actuación de atención sanitaria especial en horario escolar del año dos mil seis

porque entre otras cosas ese protocolo supedita la atención

a la voluntariedad del personal de los centros educativos y en el caso de que no haya personal voluntario en ese centro qué ocurre

un enfermero se ocupa su familia no por qué esas desigualdades entre unos centros y otros y en el caso de que acepten

atendidos por el propio personal del centro qué pasa con su responsabilidad

enfermedad que se soluciona o que se trata tomando una pastilla estos niños y niñas diabéticos dependiendo de cómo tengan su día dependiendo del ejercicio que hayan hecho

varían durante el día no es tan fácil estamos a favor de la formación estamos de acuerdo con que se forme a los profesionales pero no es tan fácil

que hay que tener en cuenta como digo no es tomar una pastilla

respuestas que nos pasó el gobierno hemos llegado a la conclusión de que el gobierno admite que estas circunstancias sanitarias educativas y sociales pueden ser un reto

la problemática existente ante situaciones terapéuticas como estas

descompensaciones que muchas veces pueden terminar en un coma diabético

contradictorios admiten que existe una problemática y eso es bueno pero tampoco hemos visto que se nos planteen soluciones orduan argazki honen aurrean

punto del pleno de hoy antes además de una campaña electoral quiero poner en valor que hayamos puesto de acuerdo a dos departamentos como salud y educación es mucho a todas las portavoces de la cámara y me parece que es importante subrayar que un día como hoy lleguemos en el último punto a un acuerdo

lo que las personas que fueron a comparecer representantes de la asociación nos pidieron nos dijeron que en un tema tan sensible como este intentásemos aparcar las diferencias políticas
y llegásemos a un acuerdo por tanto por nuestra parte felicitarnos por el acuerdo besterik ez eskerrik asko eskerrik asko blanco

gracias presidenta y buenas tardes ya a todos y a todas poco ya podemos añadir las que vamos a intervenir después de los grupos en este caso de la oposición quienes comparecieron el otro día en la comisión de salud creo que habían mantenido reuniones con los diferentes grupos parlamentarios y efectivamente nos habían explicado lo que supone el día a día no solo de los niños que padecen la diabetes tipo primero sino también

cada dos horas durante el día y la noche para que estos niños no sufran consecuencias irreversibles efectivamente esta es una enfermedad como se ha dicho aquí irreversible crónica que exige un control durante todo el día y durante toda una vida y que efectivamente hace que se tengan que involucrar las familias

los equipos docentes en los centros educativos y también los equipos no docentes que trabajan en los colegios en este caso en los jantokis que eran una de las

en este caso a las madres que vinieron al parlamento desde el grupo socialista entendíamos que sus peticiones eran razonables lógicas y entendíamos que asumibles por los departamentos tanto de salud como de educación porque desde luego facilitaban la vida de estos niños y además hacía cumplir ese principio de igualdad

ha cambiado en esto que les preocupaba que era la alimentación los colegios se han ido adaptando a las diferentes realidades

individualizado y se atiende a esa dieta que necesita o por motivo de cultura

o el caso de niños multialérgicos que también tienen cada día su menú en los colegios para ser adaptados a sus propias necesidades

de ese servicio que ofrece el departamento en este caso de educación que es dar de comer cada día a miles de niños y niñas en el país vasco

era posible acordar por todos los grupos parlamentarios y efectivamente como terminaba la señora blanco decir que era importante que esa iniciativa fuera votada por unanimidad

a poco de empezar una campaña electoral pero no solo por eso sino porque yo creo que para este tipo de cosas es para lo que sirve la política fundamentalmente

nos explicaron los diferentes puntos de hecho la iniciativa original era lo que demandaban y creo que hemos sido capaces de llegar a un texto en el que todas nos sentíamos cómodas por lo tanto si tuviera que destacar algo de todo lo que se dijo allí es verdad que el tema de la voluntariedad sí que preocupa porque

sujeto a que los responsables allí decidan o no ser capaces de hacerlo no tanto porque no quieran sino porque efectivamente

tiene importantes consecuencias y luego también el tema de las diferencias territoriales efectivamente

que tengan una situación de privilegio respecto a los alaveses y guipuzcoanos por tanto terminar

y a luke que entiendo que cambian de etapa seguirán aportando allí todo lo que
desde luego han aportado en esta cámara nada más muchas gracias eskerrik asko rojo

andrea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok eguerdi on denoi cuando un niño o una niña debuta con la diabetes tipo primero que es la gran desconocida dentro de la diabetes se produce un cambio total en su vida

porque implica una atención casi total y unos cuidados y controles que hasta entonces eran desconocidos para todo su entorno

el señor uria como profesional que es pero necesitan insulina de por vida

en cada comida teniendo en cuenta diferentes aspectos que afectan a su día a día como puede ser el ejercicio físico por lo tanto deben enfrentarse

se trata de una enfermedad irreversible el objetivo es que el paciente o la paciente y su entorno más próximo adquieran rápido para manejar la enfermedad y su tratamiento que logren en definitiva la autonomía y el autocontrol en la diabetes desde etapas tempranas como una tarea de autocuidado como así lo aconseja también la organización mundial de la salud asteartean aukera izan genuen

entendemos que se trata de casos aislados puesto que el sistema educativo público

el acceso a la educación de todas las personas por igual actualmente existen ciento seis niños y niñas diabéticas menores de diez años que son atendidos es un dato

registrado porque reciben tratamiento y son atendidos en centros escolares según esa circular del dos mil seis de la que aquí se ha hablado de atención sanitaria

desde nuestro grupo también consideramos que la circular necesita una actualización por ello hemos aprobado en el punto uno esa modificación de dicha circular para ajustarla a la nueva realidad que obviamente ha cambiado

reconocemos que se trata de un aspecto a mejorar pero también debemos destacar

a todas las persona que padecen diabetes incluso ha adoptado medidas pioneras como el sistema de

continua de la glucosa entiempo real para las personas diabéticas menores de dieciocho años que evita los pinchazos de medición previa a la administración de insulina con el

al teléfono móvil y les permite tomar decisiones y evitar mayores problemas con su enfermedad este sistema además también se hizo hace poco extensible a las mujeres embarazadas en euskadi también hay niños y niñas pequeñas que utilizan la bomba de insulina es un aparato mecánico que puede liberar insulina de forma similar al páncreas es decir una demostración de que osakidetza siempre está en la vanguardia

la mejora de la calidad de vida a sus pacientes y otro de los proyectos que tiene en marcha son los talleres cuidando mi diabetes donde aprenden a adquirir la autonomía en el cuidado de la enfermedad responsabilizarse de la salud y conocer mejor todos los aspectos de esa enfermedad respecto a la proposición no de ley finalmente hemos

ya que también yo agradezco toda la buena disposición que hemos tenido y

importante para las familias que vinieron en otro día y que nos contaron todos sus problema y que hoy tratamos

para nuestro grupo lo fundamental es esa coordinación entre el departamento de

que permita tomar medidas que atiendan a estos menores y a estas menores y que les capaciten para asumir el control de su enfermedad sin repetirme

y en el segundo punto hablamos de organizar los recursos adecuados y formados para la atención de estos niños y niñas en cuanto a la administración de insulina

que se ajuste ese menú diario a la pauta médica porque para ellos es necesaria la ración adecuada puesto que su alimentación es uno de esos cuidados principales que conlleva esta enfermedad los planes de autonomía reflejados en cuarto punto también son importantes para lograr la plena independencia

porque cuanto antes conozcan la gestión de su propia enfermedad

para ellos también hemos acordado que como indica el punto cinco

y por último dar esa respuesta individualizada y ajustada a la situación

uno de ellos y de ellas tiene sus particularidades y sus necesidades y por tanto tiene que hacerse de forma individualizada con esta enmienda de transacción ha quedado demostrado que todas y todos queremos seguir avanzando en la atención

educación para seguir avanzando en la mejora de la calidad de estos pacientes besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko molina